lehendakari sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi el objeto de la proposición no de ley de urgencia que traemos hoy al pleno

tratar de conseguir un acuerdo institucional un acuerdo amplio de consenso en torno a la necesidad de intervenir en el rescate de la naval

de una transacción entre todos los grupos era un acuerdo factible y deseable y necesario sin embargo después de los acontecimientos del día de ayer

era necesario establecer entre todos los grupos la necesidad de constituir una mesa para estudiar las alternativas de continuidad era necesario realizar un informe para respaldar la entrada del capital público en la naval

en este rescate así lo consideraba nuestro grupo que sin embargo creía que esto era un acuerdo de mínimos y lo seguimos creyendo

después de que la empresa haya presentado un ere de extinción después de que el propio gobierno vasco haya reconocido que no hay ningún inversor dispuesto a adquirir la naval

se impone la cruda realidad la cruda realidad que lleva defendiendo nuestro grupo desde hace un año preciso el rescate público unilateral de la naval por parte del gobierno vasco erreskate publikoa da irtenbide bakarra

kontu honetan la postura de nuestro grupo en todo este asunto desde hace más de un año es clara hemos sido responsables y hemos sido coherentes hemos sido responsables hasta el punto de que incluso en un acuerdo insuficiente como el de hoy no le vamos a negar nuestra firma

pero también hemos sido coherentes hemos sido coherentes desde el principio coherentes en pedir el rescate público la republificación la participación pública del gobierno en la naval y esta es la clave esta es la clave y frente a una postura responsable y coherente de nuestro grupo

referirme a cuál ha sido la postura del gobierno vasco y voy a tener que ser necesariamente crítico porque esta postura del gobierno vasco ha sido dubitativa inconsistente débil y cambiante ha sido dubitativa

que han tenido los accionistas mayoritarios durante todo este tiempo con una postura tibia de no afearles la conducta unos accionistas mayoritarios que están siendo investigados por delitos de apropiación indebida y delito societario que han sido acusados de uso e información privilegiada de adopción de acuerdos abusivos de actos contra la libre competencia del mercado y sin embargo no hemos oído al gobierno vasco a pesar de que conoce esta situación desde mucho antes de hacerse pública por parte del comité de empresa pero además el gobierno vasco ha llevado a cabo una postura inconsistente

cuando no tenía ningún informe que así lo acreditase nuestro grupo ha pedido ese informe hace un año lo volvimos a pedir en mayo y no

lo único que ha habido lo único que ha argumentado el gobierno vasco ha sido la existencia de una carta de esta carta según la cual decían que no podían intervenir en la naval no es cierto esta carta en ningún momento

que no podía el gobierno tomar una participación pública simplemente esta carta pedía información información y esto no es lo que se ha trasladado durante todos estos meses a la opinión pública pero además la postura de este gobierno ha sido débil débil porque un gobierno que tiene todas las herramientas de política industrial a su disposición las tiene que utilizar para

de la economía vasca para qué queremos el autogobierno

a decir el ridículo que estamos haciendo con la naval incapaces

para darle una solución a una empresa emblemática y estratégica

pero además la postura del gobierno y ya termino con mi critica ha sido cambiante ha sido cambiante se ha dicho el seis de octubre de dos mil diecisiete la señora tapia me dijo existen inversores señor becerra lo que pasa es que usted no los ve ayer la señora tapia ha dicho que no hay inversores dispuestos a comprar la naval no los hay

pero además se dijo que no se podía participar

se puede que sí se puede esta postura del gobierno vasco del acompañamiento

que hemos estado aplicando durante meses la hoja de ruta que era hagamos la draga tengamos veinte meses de tranquilidad consigamos un inversor privado

apoyo público esta es una hoja de ruta fallida se ha demostrado ayer mismo la hoja de ruta que hubiera sido deseable aplicar es la que ha propuesto elkarrekin desde el principio rescate público construcción de la draga llegada de inversor privado ese es el orden de los factores y no

da martxan jartzea neurri hori la cuestión de la participación pública ha sido durante todo este año el caballo de batalla del gobierno del comité de empresa y desde luego de nuestro grupo elkarrekin podemos siempre hemos defendido que la participación pública es posible

siempre hemos dicho que la participación pública era posible

tenemos que reafirmarlo con toda nuestra contundencia los tratados de la unión europea establecen la neutralidad de la propiedad pública o privada eso quiere decir que la propiedad pública nunca nunca va

intervenga en igualdad de condiciones y eso mismo

que la participación pública mayoritaria es posible y así lo dijo la comisaria en una comparecencia el veinte de noviembre de dos mil diecisiete a petición

un astillero que a día de hoy está en manos del gobierno francés y del gobierno italiano mayoritariamente mayoritariamente

las normas del tratado sobre la neutralidad de la propiedad pública o privada permiten la propiedad y el control en última instancia por parte de italia o de francia

en liquidación en liquidación que es la fase a la que nos vemos avocados y por lo tanto ya a día de hoy consideramos que no solamente es posible sino que es necesaria y que es imprescindible la toma de control del gobierno vasco o del gobierno de españa o de ambos

de un país de servicios por eso precisamente por eso a lo largo y ancho de todo el mundo gobiernos muy diversos de muy diversas ideologías han tomar parte en sus empresas desde jeremy corbyn en gran bretaña pidiendo la nacionalización de ciertas empresas hasta el señor macrón presidente de francia liberal o incluso neoliberal que diciendo una cosa

precisamente para evitar que se les vaya el astillero más grande

países emergentes y no voy a citar nombres pero hay muchos han establecido el control de sus empresas públicas para evitar precisamente que se deslocalice

porque ni siquiera quienes dicen defender el libre mercado creen en él

ni es mercado sino que es una selva donde la única ley es la del más fuerte

no es el país más fuerte precisamente que digamos y precisamente por eso nos llama la atención desde elkarrekin podemos que en el pasado debate de política general una de las preocupaciones del lehendakari fueran las distorsiones de libre mercado no podemos estar preocupándonos del libre mercado mientras

no podemos seguir acompañando a nuestras empresas hasta el nicho hasta la tumba mientras

a su desaparición si estamos pensando en crear un fondo para fomentar el arraigo de nuestras empresas de doscientos cincuenta millónes de euros

tenemos que darnos cuenta de que el arraigo no solamente consiste en intentar coger participaciones minoritarias acompañando a inversores privados

el capital privado no tiene arraigo tiene intereses el único que puede facilitar el arraigo es el capital público

tiene o no tiene arraigo yo diría que después de ciento diez años de historia la naval tiene arraigo generaciones de sestaoarras generaciones

de personas de niños y niñas que han vivido en la margen izquierda han soñado alguna vez en su día de ser remachadores oficiales de primera

la gente de la margen izquierda ha visto durante toda su historia

las botaduras las sirenas del cambio de turno todo eso va a desaparecer todo eso va a desaparecer eso es el arraigo en eso consiste el arraigo

va a pasar de tener sueños de ser delineantes u oficiales de primera a tener sueños de ser camareros o guías turísticos de los cruceros que siempre

en la margen derecha yo quisiera acabar mi intervención citando una frase curiosamente de la señora tapia cuando tomó la participación en fagor la señora tapia dijo textualmente que el riesgo de no hacer nada era mayor que el de dar las ayudas

en caso de duda tenemos que apostar por la naval no por la unión europea de duda y yo digo aquí y ahora que no podemos seguir impasibles que un acuerdo institucional como el de hoy está bien pero no es suficiente que los gobiernos vasco y español tienen que dar un paso adelante y que ya no es

es hora es la última hora de los compromisos nada

azkeneko itsasontzia es el número trescientos cuarenta y seis en la jerga del astillero se pone un número a cada uno de los barcos que se hacen

que ha llegado a dar pie a la construcción de estos trescientos cuarenta y seis barcos hay un número trescientos cuarenta y siete que está a medias en el astillero de la naval del cual pende la posibilidad de que este astillero tenga futuro ongi etorriak la navaleko langileak bienvenidos y bienvenidas trabajadores y trabajadoras de la naval y también

auxiliar que está teniendo desgraciadamente a nuestro entender menos protagonismo

en todo este debate todos estos barcos parafraseando aquella célebre

pueden desaparecer como lágrimas en la lluvia o como lágrimas en la ría es verdad que se ha hablado mucho de la empresa y a veces nos puede parecer que nos va a suceder como en el cuento de pedro y el lobo que de tanto decir que viene el lobo cuando realmente viene no nos lo vamos a creer pero desde luego como ayer pudimos comprobar el lobo está a las puertas de la naval y esta vez sí que sí no es que estemos ya pendientes de un hilo sino que el hilo se ha roto y queda una única hebra de la que pende toda

alguno de los trabajadores del comité en alguna de las reuniones que hemos tenido nos dijo que entró a trabajar en la naval en mil novecientos ochenta y que en ese momento

treinta y ocho años después la naval sigue abierta han sido muchas crisis pero como décimos podemos encontrarnos ante la última

el de la gran construcción naval no volveremos a hacer barcos grandes en euskal herria si desaparece la naval y respondiendo a lo que dijo la consejera

evidentemente no vamos a menospreciar ni el componente tecnológico ni la aportación económica

importantísimos también y cuya labor queremos poner en valor pero recordemos que este país no va a volver a hacer barcos grandes si se cierra la naval

se perderán los equipos se perderá la plantilla se perderá el conocimiento

un hotel una cafetería un hotel que se encuentra en concurso de acreedores y que probablemente no subsistirá al posible cierre de la naval de eso estamos hablando cuando hablamos también de empleo indirecto quiero mencionar a las cuatrocientos cuatro empresas al menos cuatrocientos cuatro empresas proveedoras que trabajan para la naval empresas

que el de los propios trabajadores de la empresa empresas como gs hydro o pine

que en el caso de que se cierre la naval

nos cerraron las grandes fábricas y se olvidaron de nosotros

son para muchos en este país el lejano oeste el lejanísimo oeste de bizkaia y de euskal herria al que no han llegado las políticas públicas

y todavía hay ahora quien insiste en recalificar terrenos industriales para abrirle la puerta a amazon si ese es el futuro que nos depara a la margen izquierda las instituciones actualmente creo que tenemos que levantar la voz y no permitirlo y no permitirlo solo un dato sestao mil novecientos ochenta y uno cuarenta mil habitantes sestao dos mil dieciocho veintisiete mil habitantes es un pueblo que se va a pique también junto con

que había allí y no es casualidad que no me voy a remontar mucho solo voy a dar el nombre de unas cuantas empresas

porque se ha tratado su situación aquí empresas de la margen izquierda

general electric acb la naval empresas que están viviendo crisis porque en la margen izquierda

están pasando por momentos de dificultad de forma cíclica no se ha invertido alrededor de estas empresas no se ha creado un tejido de nueva industria de nueva industria avanzada y tecnológica que permita

casi la mitad de su población en treinta años volver ahora

supone lisa y llanamente una tragedia

akordio hau ez dela nahikoa eta akordio honi gauzak gehitu egin behar zaizkiola hemos firmado un acuerdo de cinco puntos como decía anteriormente sobre lo que nos une que aunque no

y merecía la pena a nuestro entender articular un consenso sobre ellos aunque evidentemente hay otras cuestiones

en primer lugar en el acuerdo se recoge una mención a la situación de la margen izquierda

y se recoge la necesidad de apostar por la defensa de la industria en la comarca

naval un sector estratégico y que ponga todos los medios incluyendo la inversión económica directa para salvar al astillero de la naval

la constitución de esa mesa multipartita en el que todos los agentes que están afectados por la problemática se sienten y de una vez por todas

no existe y se pide también un informe jurídico que dé respaldo y que dé viabilidad a todo esto que estamos haciendo porque a nadie se le escapa y el señor becerra también ha insistido

sobre la cuestión jurídica es decir no podemos hacer y todos somos conscientes de que no podemos hacer lo que queramos de que no podemos sacar la chequera y comprar el astillero así como así sino que hay que cumplir con una serie de requisitos lo que no estamos de acuerdo entre los grupos parlamentarios es en cuáles son esos requisitos y si está imposibilitada

pública o hasta qué punto está autorizada nosotros no queremos actuar con frivolidad nosotros sabemos que en este caso sin ir más lejos en el caso de los astilleros

no consideró ajustadas a derecho y que eso llevo a una situación muy complicada nosotros no queremos frivolizar ni queremos hacer demagogia nosotros queremos rigor y queremos hacer las cosas bien

de forma demagógica que se arregle el asunto simplemente sacando un cheque por parte del gobierno vasco

respaldar que respalde lo que queremos hacer y lo que queremos hacer es garantizar mediante la intervención de los poderes públicos si es necesario

pero también desde los poderes públicos queremos invertir y queremos apostar por este astillero porque no vale hacer un informe para decir que no podemos hacer nada se lo hemos dicho y se lo digo por tercera vez

yo imagino que aquí en esta sala habrá unos cuantos abogados y abogadas en mi grupo hay varios la señora castelo

les voy a hacer una pregunta en el ejercicio de su profesión como abogados y como abogadas alguna vez se ha presentado alguien en su despacho y les ha dicho oiga señora goirizelaia o señora ugarte

vengo a contratarla a usted pero no hace falta que me dé la razón usted estudie el caso actúe como mejor proceda en derecho y si la razón la tiene la otra parte pues oiga yo le voy a pagar igual esto no pasa en la vida real esto no pasa verdad señora castelo usted cuando va

a su despacho lo que le pide es que defienda sus intereses y nosotros queremos hacer un informe jurídico no para que nos diga lo que no podemos hacer sino para que nos respalde con seriedad evidentemente y sin inventarse cosas pero para que nos respalde la posibilidad de una intervención pública una intervención pública que hasta el momento

por lo menos hasta un cincuenta por ciento estamos todos de acuerdo en que se puede hacer y también por último en este acuerdo se pide al gobierno central que actúe con responsabilidad decía antes el señor becerra y en esto no puede estar usted de acuerdo hace una mención yo creo mesclando un poco churras con merinas el autogobierno de bruselas o no bruselas hombre

de españa el señor alonso nos dirá que para el tav y para la guardia civil sí pero en ezkerraldea sabemos para qué hemos tenido el gobierno de españa para cerrar los altos hornos y para cerrar euskalduna

por eso con amigos como esos quién necesita enemigos

que se escabulla de su responsabilidades eta azkenik

a la única carta de la aparición de un inversor privado ayer usted señora consejera se refería a ese inversor en términos que yo creo que resultan hasta hirientes

el futuro del astillero de la naval no puede pender de mirlos ni de unicornios

y todas y si no aparece el inversor privado

usted no se puede pasar como se ha pasado el último año y pico como los personajes de aquella novela

usted no puede seguir esperando a godot usted no puede seguir esperando al inversor porque perdóneme el spoiler la obra terminado y los personas que se han pasado toda la obra esperando a godot ahí siguen y godot no ha aparecido

qué nos vamos y dice sí y siguen sentados es célebre porque representa lo que es absurdo en el teatro pero es que desde luego no podemos hacer es

si no aparece y si es necesario es partenariado con agentes privados creen

creen una sociedad privada ayuden a que se cree una sociedad privada desarrollen una interlocución con los agentes del entorno socioeconómico vasco para que se cree esa

que pueda invertir y a la cual el gobierno vasco puede acompañar y yo creo que estamos de acuerdo al menos hasta el cincuenta por ciento quizás más pero al menos hasta el cincuenta por ciento estamos de acuerdo no se queden esperando a godot porque si godot no aparece la naval se cierra

buenos días señora presidenta señor lehendakari hoy parecía que podía ser un buen día porque había un acuerdo unánime de todos los grupos en una materia tan importante

no hacen precisamente que sea un buen día y yo aquí tengo que decir que es algo sorprendente que estemos hablando de un astillero en problemas

y en el país vasco va muy bien todos los astilleros van muy bien todos los astilleros ganan dinero todos tienen carga de trabajo

que se va a cerrar del que conocimos nosotros algunos problemas hace dos años no por parte de los empresarios sino por parte de los trabajadores cuando nos dijeron que se les acababan los diez años de garantía para volver a navantia

que se fueran ciento ochenta a navantia y la naval se quedara sin trabajadores y cuando menos suena extraño que digamos que la empresa no parecía en nada preocupada en eso nosotros sí nos preocupó y evidentemente nos movimos también nos sorprendió otra cosa cuando fuimos a madrid el señor alonso y yo a hablar de este tema

no les importaba recibirlos no tenían problema con esos trabajadores precisamente que yo creo que es una prueba más

con una tecnología importante con unos trabajadores importantes y que además hace barcos importantes y que da trabajo

a la diputación foral y al gobierno vasco porque cuando se construye un buque un barco de cuatrocientos millónes de coste habría que ver cuántos son irpf cuánto son iva y cuánto son otros impuestos que recaen en el coste de ese barco pero bueno

esa situación se arregló me acuerdo que la empresa no estaba en pérdidas pero lo mismo que nosotros sabemos esto porque tampoco somos

primero acude al gobierno y luego

generalmente vienen al partido popular cuando ya no

pero bueno nosotros y hace un año hablamos con el lehendakari que parecía que era la primera vez que se enteraba que había problemas en este astillero cuando empezaba a haberlos

me sonríe la señora consejera pero han pasado dos años desde aquello dos años desde aquello había creo recordar que había cinco buques en la cartera de trabajo

el problema no era la carga de trabajo tenía carga de trabajo

no era ese el problema el problema es otro que la gestión ha sido nefasta es evidente de los propietarios

no sé lo que ha sido ni la voy a calificar porque no es el problema pero

que se van a recolocar en navantia pues no parece que tengan un gran problema hombre preferirán vivir en sestao que tener que irse a otros sitios como todo el mundo pero claro no son el problema el problema es que perdemos un sector entero

la señora consejera sabe y el lehendakari sabe que estamos hablando de un sector de construcción naval muy importante y que cuando se cierra un astillero grande

en europa es muy complicado que se vuelva a abrir uno nuevo

prácticamente imposible y eso lo sabemos todos pero si además si además se pierde el capital humano que es el que sabe hacer los barcos

la señora consejera comprenderá mi escepticismo de que una vez que despedimos a todo el mundo una vez que se cierra todo una vez que llega alguien y dice ahora ya no hay deudas y ya está todo tal ahora entro yo y allí hay un solar

y eso no puede ser un proyecto o la continuidad de un proyecto será otra cosa pero no da la sensación de que vaya a ser una continuidad de ese sector y de ese negocio de construcción de barcos

o por lo menos no nos lo parece ahora tengo que reconocer que sí que nos parece bien

la señora consejera me preguntaba qué significaba articular pues parece que ya hemos entendido todos lo que significa articular y en la enmienda de transacción

que para nosotros es muy importante de toda la enmienda y por eso nuestra enmienda iba

articule junto con el sector privado una alternativa que garantice su debilidad industrial y económica

esta comunidad autónoma alguien lo ha dicho antes que reclama siempre muchas competencias

tenemos la competencia fiscal tenemos fondos varios fondos de inversiones de todo tipo

capacidad inversora como no recordaba el otro día el lehendakari

hace poco hemos creado un fondo que se suponía que era para invertir en empresas vascas emblemáticas importantes y al final recompramos acciones que vendía kutxabank pero bueno

importantes de este país tenemos todos esos materiales y es evidente que con esas materiales que tenemos y con el sector empresarial que tenemos este gobierno como otros gobiernos anteriores son capaces de articular propuestas para proyectos viables porque tiene que ser viable y económico por qué no estamos hablando de salvar un astillero hoy para que pasado mañana se desde luego no estamos de acuerdo con lo que nos planteaba desde podemos de que la única solución

porque es evidente que esa no es la solución ese es el cierre definitivo y además con sanciones económicas desde bruselas nos guste o no nos guste esto funciona así

articular un proyecto viable que salve esa empresa y que mantenga

pero cuando no quede nadie allí de qué estamos hablando es la pregunta que yo le

pero el gobierno de españa aquí tiene las mismas competencias perdón menos de las que tiene la señora consejera por tanto

está muy bien pero en este caso repito tenemos las competencias

no necesitamos a nadie lo dije el otro día en este aspecto funcionamos como un estado miembro más de la unión que tenemos que cumplir los mismos requisitos que los demás estados

qué ha hecho en la margen izquierda yo señor casanova a lo mejor como es más joven

las prejubilaciones de todos los trabajadores de todas esas empresas que fueron miles cientos

que pagaron todos los españoles para que los trabajadores de la margen izquierda se pudieran prejubilar algunos con menos de cincuenta años

y a decir las cosas pues yo creo que hay que decirlas todas y yo solo espero que no tengamos que volver aquí con este tema

porque la señora consejera y este gobierno con el lehendakari a la cabeza y el diputado general de bizkaia han sido capaces

de articular un proyecto que sea viable económicamente que cumpla los requisitos de la unión europea y que salve la naval y el sector auxiliar

me preguntaba el señor casanova o nos interrogaba a los abogados que podemos ser parlamentarios de esta cámara qué hacemos cuando nos viene un cliente al despacho

estudia el caso y no vende falsas expectativas no le vende humo porque puede ser que a la defensa de sus intereses tenga solamente un camino y no el

usted ha tenido una visión bastante más realista del problema y sabe perfectamente que el primer paso a dar

aquí hay gente que sale y ya tira la toalla parece que nos ha pillado de sorpresa el hecho de que se haya conocido ayer de forma pública que podría haber un ere de

que ya lo sabíamos desde por lo menos la semana pasada igual es que hay que estar un poquito más en el contacto en vez de llenar lo que es el discurso de diez minutos pues aquí lo que tenemos que hacer es tener las cosas claras usted ha tenido una postura bajo mi punto de vista más coherente sabemos perfectamente que el primer paso a dar

y yo no venderé falsas expectativas tampoco aquí es que haya carga de trabajo

para que la actividad siga y para que sea un astillero interesante para la búsqueda la articulación el encontrar el pintar llámenlo ustedes como quieran porque a mí me da igual un inversor que junto con el gobierno vasco

entren en los activos de la naval y tengamos una opción de futuro para esta empresa por tanto eso es lo que hace alguien con honestidad cuando no quiere engañar decir por dónde se puede caminar y por dónde nos podríamos

este parlamento siempre se ha pronunciado y ustedes lo han dicho de forma unánime en apoyo a la naval de

y me ha dado la sensación por la intervención del portavoz de podemos que no cree en el acuerdo que estamos llegando aquí por mucho que nosotros aquí todos los grupos políticos llenemos diez minutos de conversación eso no va a ser lo importante para el futuro de la naval lo importante va a ser que el gobierno vasco y que el ministerio de industria tengan

y que consigamos que el contrato de la draga vox alexia esa draga sea la siguiente que salga del astillero de la naval eso es

va a lograr salvar la naval por tanto yo creo que el acuerdo que teníamos era un acuerdo no de mínimos sino con una ruta fija y clara algo que no debió de interesar tampoco a alguno de los grupos que hoy han intervenido aquí haciéndose como los sorprendidos de la situación o de la gravedad porque hace un año hace un año hubo alguna otra iniciativa

ahora de repente entra las prisas por la naval pero es que hay gente que estamos trabajando con ellos no ahora

sino años y años atrás con ellos para solventar todos los problemas porque el lobo se ha acercado a la naval en muchas ocasiones no es la primera

dígase ere de suspensión de contratos hasta ocho acumularon aquí

retroceda y esta no queremos que sea una excepción nosotros estamos hablando y lo sabemos de una empresa que remonta

a cien años de historia una empresa con un potencial industrial imprescindible e innegable

no me puede decir usted aquí y menos a mí con treinta y ocho

en sestao cual es la vinculación de nuestro pueblo con esa y con otras empresas es decir es muy difícil que alguien que lleva toda esa vida en sestao no tenga

un vecino un amigo que no esté vinculado a la empresa antes

el pueblo se vuelca con esa empresa la comarca se vuelca con esa empresa porque sabemos que nuestro futuro como pueblo y nuestro futuro como comarca pasa por el futuro

a este parlamento absolutamente nadie lo tenemos muy claro es verdad que la construcción naval y lo décimos también en el acuerdo porque creemos que es importante es un sector estratégico

creemos que es necesario volverlo a proclamar hoy lo mismo que hicimos hace unos meses cuando hemos intentado hacer unas conclusiones sobre la ponencia de la situación de la margen izquierda no tenemos un sector el naval que es generador de empleo directo

sino también social y eso para nosotros también es muy importante y eso es lo que significa para mí

la naval de sestao y es verdad le digo que hemos atravesado obstáculos importantes ellos lo saben desde su creación siempre

pero aún en el tiempo de descuento lo hemos podido superar y es verdad que hoy nos encontramos en un tiempo difícil lo decía iker el viernes pasado

sí sí que es cierto que está en naranja pero todavía está en naranja y no podemos tirar la toalla hay poco tiempo pero también es cierto lo ha dicho iker no lo ha querido reconocer josé ramón pero también es cierto que hay una voluntad y bajo nuestro punto de vista sincera de las administraciones públicas en este momento para dar una solución a la naval para dar una continuidad a la actividad

de la cámara y lo hacemos de una forma sincera y no me voy a cansar de decirlo para que el gobierno vasco para que la consejera y para que el lehendakari redoblen sus esfuerzos para garantizar

y ocupado en intentar dar una solución a la naval un paso más le estamos pidiendo hoy al gobierno que tome participación directa en los activos de la empresa le estamos diciendo hoy al gobierno que entre en el futuro de la empresa para garantizar

viable para el astillero los trabajadores esto lo tienen claro si no hace falta que se lo digamos nosotros nosotros los socialistas también lo tenemos claro ya en el año dos mil once con el lehendakari patxi lópez a la cabeza

aunar las voluntades de las diputaciones forales y del gobierno para entrar en el accionariado de la naval y poder así desde dentro y con un control público

aquí en el año dos mil catorce del comité de empresa cuando nos venían a contar que tenían problemas todavía porque no firmaban carga de trabajo el tax lease acordaros que tenían que hacerse las devoluciones los cálculos etcétera

es que tenían un consejo de administración unos accionista que decían que eran un y eso es un poco lo que ha pasado aquí la responsabilidad también la tenemos que tener clara ha habido una nefasta gestión del astillero

a dar viabilidad y futuro a una empresa bueno pues ese grupo de empresarios vascos alabado en su inicio ha sido nefasto en su gestión

ya en el dos mil catorce los sindicatos el comité de empresa nos dijo que se comportaban como un auténtico

pero en aquel dos mil once cuando lo intentamos los accionistas no lo dejaron hoy estamos en el dos mil dieciocho

no van a tener ese derecho de veto que tuvieron entonces los accionistas en este momento sí es posible que podamos decidir la entrada en el astillero desde las administraciones públicas

lo que pasó en otras circunstancias en otros momentos y con otro tipo de ayudas desde luego desde la legalidad pero también desde el convencimiento y la firmeza de que ese es el camino que teníamos que seguir lo decía el presidente del comité de empresa este domingo en un medio de comunicación y yo

que podemos perder las noticias no son buenas y no nos hemos enterado ayer

sabiéndolo un cierto tiempo y la naval va de obstáculo en obstáculo y la cosa sí que es verdad que no pinta

entre todos con sinceridad entre todos somos capaces de jugar bien el último balón antes de que termine el partido y eso es lo que yo le quiero pedir a la consejera tapia y al señor lehendakari tenemos un tiempo de descuento en el partido

para que la naval siga teniendo futuro necesitamos en la comarca lo necesitamos los sestaotarras necesitamos que la naval siga con nosotros por eso les pido

para conseguir que el astillero siga siendo una realidad para los sestaotarras de hoy y de mañana

en una rápida mirada en diagonal al historial de este parlamento me he encontrado centenares de documentos referentes a la naval preguntas interpelaciones comisiones y proposiciones no de ley y siempre siempre han sido para defender la supervivencia de la empresa ante diversos avatares y siempre

se sustanciaron en esta cámara dos preguntas y una interpelación

de desarrollo económico de tal manera que yo entendí que este debate podía haber finiquitado pero se ve que no y además se ve que nos estamos reiterando prácticamente todos

extinción con un consejo de administración ausente un armador dubitativo

las ubicará de manera diferente y donde entienda oportuno pero por mucho que lo debatamos no encontraremos solución a este problema que es de lo que hoy se trataba aunque insisto en momentos de más calma ahondar en las responsabilidades tampoco vendría mal

que si los propietarios se hubieran involucrado más y mejor los bancos hubieran confiado mejor y el armador del buque

eta epe ertainean etorkizunerako konponbide bat aurkeztu ahal izateko nuestro grupo y el grupo socialista hemos abordado con nuestra enmienda

porque además nos ha impulsado en serio un intento de llegar a un acuerdo creemos más que sinceramente en un acuerdo amplio es mejor que trocear

en diferentes visiones de la solución y del tratamiento que haya que dar a este asunto porque desde el principio hemos sabido que solo un acuerdo amplio de esta cámara permitirá a los trabajadores de la naval si no ver una solución inmediata sí visualizar para pedirle a la administración un camino a seguir un camino unánime en este caso

porque para que cada uno encuentre su identificación no sé en un pedazo de la izquierda troceada que hay ahora en estos momentos siempre habrá tiempo y oportunidades

porque todos estamos de acuerdo con que el sector naval es estratégico y tractor de la economía vasca y si bien la naval no es la única empresa del sector que otras hay su posible desaparición es verdad que sería un duro golpe aunque déjenme aprovechar

también de altas tecnologías y altas prestaciones y que por ciento no hacen precisamente ni txalupas ni traineras un sector que ocupa a trece mil setecientos personas en total y que en dos mil diecisiete facturó más de dos mil ochocientos millónes de euros eta gainera guztiok bat datozelako

no quiere decir que algunos no lo vengan haciendo ya desde hace tiempo y de una manera continua porque a todos nos consta menos a los que no les quiere constar que la relación entre el departamento que dirige la señora arantza tapia y el comité de empresa ha sido continuo lo mismo que con los accionistas la gerencia los bancos

fuera de las oportunidades más o menos urgentes de otros gobiernos de otros el gobierno el lehendakari y departamento de desarrollo económico con su consejera a la cabeza

acompañando trabajando en la búsqueda de soluciones impidiendo acciones irreversibles y buscando accionistas y no solo cuando viene la oposición a preguntar o criticar no sé qúe inacción el gobierno ustedes y el comité de empresa lo saben lleva trabajando y acompañando sin parar para buscar soluciones al problema quizás quieren hacer creer a alguien desde una visión oportunista

y miren ni es verdad ni les van a creer pero claro incluso ahora resulta que acompañar parece nada y se ironiza sobre el concepto cuando acompañar

ir en compañía de otras personas existir junto a otra o simultáneamente con ella o participar de los sentimientos de alguien que no es poco en este caso además de la parte emocional que insisto no es baladí acompañar es estar junto a quien está mal ayudarle buscar con él soluciones a su conflicto o retrasar las actuaciones de los demás que puedan perjudicar al acompañado les parece poco acompañar y mientras el gobierno trabajaba

hablaba con todos los que algo tenían que decir demoraba acciones que podían dar al traste definitivo con la empresa o buscaba inversores otros llamaban al gobierno fundamentalmente para pasar a ser su propietario y cuando el gobierno respondía que en función de las normas comunitarias resultaba ilegal y por tanto imposible se le contestaba desde la oposición que no se hacía nada

siempre que hubiera un plan de viabilidad y en veinticuatro horas recibió una carta de la ue requiriéndole información y abriendo un expediente informativo se volvía a decir que no se hacía

no podía recibir ayudas públicas y obviaban que la naval estaba en concurso de acreedores

podemos darle todas las vueltas que queramos pero la verdad es la que es y hasta el momento no se ha podido efectuar esa aportación de dinero público porque la normativa es

se pueden desgallitar criticando lo que no se ha hecho que no se podía hacer y callando lo que se ha hecho lo que se podía hacer que entre otras cosas ha consistido en presionar para reconducir posiciones de todos y de esa manera alimentar la posibilidad de arreglo

y con esperanzas de rehacerse es porque el gobierno vasco ha estado ahí acompañando a partir de aquí y cuando se proceda a la liquidación de la empresa se puede volver a empezar

y con disposición de poder ser reflotada con la posibilidad de que pueda venir un inversor fiable con un plan de viabilidad y ahí sí ahí puede que las administraciones

siempre que no superen el cincuenta por ciento del total que eso sería publificarla porque en los últimos tiempos se ha venido hablando con exceso

se tratara de publificación de la naval que saben

al tiempo que sugiere un debate muy interesante sobre un método y un peligroso precedente porque yo voy a preguntar voy a arriesgar un poco

independientemente de lo estratégica que la consideremos muchas otras empresas han pasado y seguramente pasarán por la misma situación y la solución no parece ser publificarlas en convertir a sus trabajadores en funcionarios para qué si no existe ni un plan de empresa ni de futuro a administración hombre puede tener fondos los de todos y todas para ponerlo en una empresa pero no es el gobierno la función del gobierno solucionar los problemas de gestión

hecho el inciso hoy hablamos de tomar decisiones que son de seguir acompañando y buscando soluciones

pendiente de construcción se finalice acompañar en seguir buscando un grupo inversor fiable capaz de retomar la marcha de la naval o como dice el señor damborenea

y después acompañar con ayudas o con la propia presencia de las administraciones en el consejo de administración y así lograr que la solución no sea coyuntural

resulta imprescindible que existan socios referenciales que sepan del negocio y que en casos como este la administración pueda aportar fondos y acompañar la gestión otra vez acompañar

lo hace y lo hará con la naval en fin en definitiva aunque parezca que no estamos muy satisfechos de la unanimidad que hemos conseguido en el documento que hemos firmado y simplemente le diré como dijo albert camus no camines detrás de mí

no camines delante de mí puedo no seguirte simplemente camina a mi lado acompáñame y puestos por si a alguno le vale ahí le queda lo que dijo el escritor a victoria schwab la política es agotadora

lo es no físicamente pero últimamente para la paciencia enorme la política es agotadora pero acompañada puede ser agradable hoy

acompañar a quienes lo necesitan muchas gracias eskerrik asko tellería jauna

no sirve para mejorar la vida de la gente y no sirve para mejorar nuestro tejido económico

si tenemos todas las competencias en política industrial y no las aplicamos

pero yo no voy a defender por supuesto ni el papel del gobierno de españa

ni a quienes pretenden reducir el autogobierno solo pretendo que se utilice nuestro grupo nunca ha hablado señor damborenea de nacionalización y tampoco ha hablado mayormente de publificación como dice el señor tellería hemos hablado de rescate rescate público que es

tomar participación y lo hemos dicho temporal o permanente mayoritaria o minoritaria desde el principio lo hemos dicho

ni con demagogia ni con alarmismo lo hemos hecho con todo el rigor que hemos podido dentro de nuestro grupo hemos pedido los informes jurídicos más de una vez señor tellería hasta dos veces he tenido que pedir este parlamentario amparo a la mesa

la cuestión es la participación pública cuándo cuándo sí y cuándo no dice el señor tellería por qué no en cualquier empresa porque cualquier empresa no es

por lo tanto la naval sí porque es estratégica y porque es viable

mientras tuvo una dirección medianamente decente y cuando dejó de tener una dirección decente

la pregunta señor damborenea es qué pasa si no hay inversores privados

y ante la duda nuestro grupo lo tiene claro adelante adelante no hemos encontrado dentro de nuestras modestas posibilidades ningún impedimento para que la participación sea mayoritaria evidentemente en la fase de liquidación en la fase de liquidación cuando la empresa como ha dicho el señor tellería deja

ha sido sincera o no eso forma parte de lo subjetivo tengo mi propia opinión pero cuando usted ha dicho que ha sido firme le digo que no y yo he dado cuatro adjetivos dubitativa inconsistente débil y cambiante

acomplejada acomplejada porque es cierto que han intentado hacer cosas pero en cuanto la unión europea ha preguntado por la naval

al ministerio le llegó al ministerio efectivamente fueron por las declaraciones del señor lehendakari lo único que hizo la unión europea fue preguntar

eso es lo que hizo la unión europea y ante eso dimos marcha atrás y nos cuadramos y eso no puede ser usted

ha hecho una relación de los responsables los accionistas los bancos el armador yo me he limitado a relacionar desde mi punto de vista cuáles eran las responsabilidades del gobierno que no han incumplido pero todos esos que ha mencionado usted miran por sus intereses miran por sus intereses

y por eso le pedimos un compromiso un compromiso que no una voluntad señora castelo un compromiso ustedes los socialistas

tiene una buena oportunidad quinto punto de la resolución de hoy vaya a madrid hable con su gobierno que lo tienen desde mayo y dígale que ya que es

pues que traiga carga de trabajo porque si no tenemos un armador privado por qué no vamos a traer carga de trabajo de construcción naval civil

y entonces y solo entonces háblennos a nosotros de populistas de demagogos y de todo ese tipo de cosas claro que queremos este acuerdo

insuficiente porque a la vista de los datos de ayer ya no queda tiempo no hay inversor y en dos semanas no habrá plantilla qué hacemos entonces

desde luego tiene el aval del grupo parlamentario de euskal herria bildu para que el gobierno se implique al máximo apoyando

empresa de una comarca desfavorecida en términos socio económicos y representen a un subsector del cual sean el único componente

en general tienen nuestro apoyo para apoyar a todas las empresas a cada una en función de sus necesidades y si tiene varios hijos sabrá que el jarabe se le da al niño que está enfermo

entonces en este caso el enfermo y muy grave es la naval por su dimensión por su ubicación y por su subsector

pero insuficiente no hay que sobrevalorarlo diciendo que es la hoja de ruta definitiva ni hay que negar los avances que supone supone avances a nuestro entender la oposición del gobierno y de los partidos que le respaldan porque hay un compromiso de acudir

del capital darle el máximo respaldo a la naval darle respaldo jurídico y sin incurrir en

prohibidos pero sí es verdad que se puede pedir que haga un trabajo favorable a los intereses de quien lo encarga porque yo mire este grupo parlamentario no tiene en este momento un informe jurídico avalado por los mejores abogados

lo que estamos pidiendo y nuestro grupo defiende el sector público y defiende un sector publico industrial y cree que puede haber un rescate y cree que puede haber una intervención y que puede ser hasta el cien por ciento lo cree pero entiende que hay un debate jurídico al respecto

es que ese trabajo jurídico se haga por parte de los expertos y que lo encargue quien tiene los recursos para encargarlo que es el gobierno vasco nosotros desde un punto de vista político y económico sí defendemos un sector el público e industrial y creemos que puede haber más intervención

no existe en todo caso y como decía por lo menos hasta el cincuenta por ciento ya nos hemos puesto de acuerdo

en boca del gobierno y también es una novedad que se acceda a crear la mesa multipartita que durante todo este tiempo se ha estado negando y usted decía había otras iniciativas que se han aparcado efectivamente se han aparcado por prudencia porque aquí el objetivo

y que le den la medalla de hojalata al mejor orador o al que ha dicho las cosas con más salero

cuando estaba pendiente de ese hilo todo el mundo estaba de acuerdo en que el balón de oxígeno que necesitaba de forma vital era

y en ese momento es verdad que no se quería mezclar un debate político no se quería que el ruido político alterara esa decisión que era una decisión que dependía de varias partes en última instancia de van oord pero también de unas negociaciones muy complejas con la banca con la dirección del astillero y demás y en ese sentido

prudencia hemos sido prudentes pero no traemos esto ahora por capricho ni porque

antes de que sea demasiado tarde tenemos que exigir que se haga lo que se tiene que hacer por eso hemos venido ahora y por eso hemos sido prudentes anteriormente no porque no hayamos hecho un seguimiento permanente de la situación sino porque intervenimos en el momento en que creemos que nuestra intervención

que va a aportar algo y creemos que algo ya ha aportado porque como decía anteriormente las posiciones del gobierno se han movido y se han movido por la presión social y también por la presión política decía el señor damborenea que claro que el gobierno de españa hizo mucho por la margen izquierda pagar las prejubilaciones hombre conozco el caso mi padre era uno de esos prejubilados

unas buenas condiciones para los trabajadores y trabajadoras a cambio de cerrar las empresas

pero el resto dónde está dónde están los puestos de trabajo dónde están las empresas hubo un desmantelamiento industrial sistemático sistemático de toda la gran industria de la margen izquierda y eso lo hicieron fundamentalmente los gobiernos centrales

y con nuevas industrias y es verdad y terminamos con ello que

pero no lo han hecho del todo bien o en el mejor de los casos tendrán que reconocer que no ha sido suficiente porque ayer mismo decía usted señora consejera

o por lo menos admita que es insuficiente y lo que estamos planteando aquí es de forma constructiva qué es lo que se puede hacer qué es lo que se puede hacer y si ustedes dicen que es imprescindible ese inversor privado

eh bildu también defiende que el dinero público se tiene que gestionar con rigor

esto no es un sector condenado como se ha dicho anteriormente esta es una empresa que bien gestionada puede ganar dinero esta es de todas las empresas en crisis que hemos tratado en este parlamento en los últimos tiempos es la única empresa que no se muere de inanición se muere de indigestión

y por tanto es una empresa que tiene viabilidad en términos económicos y por tanto estamos diciendo que el dinero público que se vaya a invertir ahí no solo es dinero bien invertido en términos sociales sino también en términos económicos y si el socio no aparece haga usted para que aparezca hágalo hable

interlocute con los agentes sociales y consiga que ese socio aparezca y sino que se cree

que qué pasa si no llegan los mirlos blancos yo como no creo en los mirlos blancos

eran negros pues no me planteo nunca esas cosas y por eso nosotros desde el principio dijimos

a que articulara una posición conjunta

porque se puede hacer ahora bien usted me decía que no habla de nacionalización bueno llámele como quiera pero si al final entra el gobierno vasco o una administración pública y compra el cien por ciento de una empresa

es muy de izquierdas y por cierto no funciona porque nos decía el señor casanova que

pues yo no sé si compró la paz social pero en este caso fíjese usted que no solucionamos nada porque la paz social se van a ir a navantia o sea no tiene usted este problema

o publifica o pongan la palabra que quiera en este caso la naval y no solucionan ninguno de los problemas del sector auxiliar ninguno

todas las empresas que están alrededor por lo tanto no es la solución y desde el principio sabemos que no y yo lo que remarcaba es que

pero este año dos mil dieciocho que todo el sector naval español vasco

están todos los astilleros fenomenal todos trabajando todos con carga de trabajo todos ganando dinero hacen entrevistas

en los últimos quince o veinte años los públicos también funcionan bien y casualmente en el año en el que en europa bueno los públicos como dice la consejera que no no lo sé pero vamos los privados

y este era privado están todos encantados consigo mismo de cómo les van las cosas y nosotros resulta que estamos hablando de que el más importante de los privados que tenemos

el tema es el que es es un sector que evidentemente es viable es un sector económicamente viable y lo están demostrando todos los astilleros

este mismo astillero era viable y ya se ha dicho aquí tenía carga de trabajo suficiente para más de diez años y sin embargo la gestión que no ha sido nada buena nos ha llevado a esta situación que yo no sé si es buscada o no es buscada

en lo que hoy estamos yo creo que el acuerdo al que hemos llegado es bueno yo lo que espero de los acuerdos buenos cuando son unánimes

pues esperemos que se cumpla y esperemos que el gobierno vasco

evidentemente es el principal responsable y el que tiene los mecanismos junto con la diputación de bizkaia los tiene todos fiscales económicos industriales todos para poder plantear un proyecto viable económicamente

en el astillero de la naval y que siga tirando de la economía de toda esa zona y

es que se pueda poner las medallas cuanto antes porque lo ha hecho muy bien lo ha gestionado ha descubierto que articular significa juntar varias cosas

en el mes de diciembre eskerrik asko damborenea jauna euskal sozialistak

señor becerra usted ha dicho rescate público

tomar participación pública mayoritaria o minoritaria

y luego ha dicho un poquito más adelante tras la salida de la crisis

la consejera también el viernes más o menos lo que ponemos en la enmienda

que podemos hacer cuando usted dice rescate público y alienta falsas expectativas no está siendo honesto con ellos porque un rescate público no significa y creo que se lo ha dicho iker no podemos sacar el cheque llegar a la administrador concursal y decirle

no no es cierto y lo sabe tengan o no tengan el informe jurídico es decir que hay dudas y que necesitamos seguridad jurídica eso también lo reconocemos

actúe en esta empresa no es como cualquier otra empresa es que de esta empresa también depende el desarrollo de una comarca y en este parlamento hemos conseguido una unanimidad para decir que el desarrollo de la comarca de margen izquierda y ayer estaban todos los alcaldes de distintos símbolos políticos

de perder a la naval no nos podemos permitir el lujo de seguir perdiendo tejido

con cierta coherencia desde el ayuntamiento todos los grupos políticos que están en el ayuntamiento y es garantizar que no va a ver recalificación de terrenos industriales

para el sector naval y que va a seguir siendo así para que no haya tampoco

eso ya lo hicimos en un momento determinado en la anterior crisis de la naval lo hemos hecho otra vez ahora y

en sestao se confía y se cree en el desarrollo industrial y en las necesidades de desarrollo industrial usted es hijo

de altos hornos bueno yo soy de la naval mi padre es jubilado de la naval y mi tío es jubilado de euskalduna en aquel momento en la reconversión y tengo otro tío

y también lo he tenido en general electric y también lo he tenido en la babcock wilcox y hemos vivido y sabemos perfectamente lo que significa para la margen izquierda los procesos de reconversión

nadie nos puede enseñar lo que significa la lucha

no hay que confundirlo con la discreción y la prudencia que a veces aconsejan a las gestiones que se tienen que realizar para conseguir determinados acuerdos y yo creo que usted sabe o debería de saberlo porque aquí se lo han dicho y lo habrá escuchado

sí se han producido porque se lleva un año en la búsqueda de personas que sí han visitado el astillero con diferentes intereses

posibilidades y lo hemos dicho en nuestro acuerdo si no

y lo dice el acuerdo articúlese un inversor privado que acompañado por la participación de la administración pública dé viabilidad al astillero si aquí no es una cuestión de ponerse medallas si se la quiere poner la señora consejera perfecto sino el lehendakari yo regalo las medallas a quien quiera

de la empresa y los socialistas no damos lecciones señor becerra no se equivoque no damos lecciones pero sí es cierto que tenemos una cosa muy clara y ese es cuál es nuestro compromiso

es de hechos y desde hace muchos años o es que se piensa usted que hemos esperado a que me lo digan en esta tribuna para que el ministerio de industria ya haya empezado a tener reuniones o es que cree usted

o es que cree usted que el ministerio de industria no ha tenido ya reuniones con otras

los socialistas desde hace mucho tiempo en concreto con la empresa la naval tenemos un compromiso sincero se lo he dicho

en la dirección en la que ellos quieren que vayamos y seguiremos haciéndolo por tanto no debería

que hubiera un compromiso lo que tendría que estar usted es detrás nuestro también y empujando en la misma dirección con convicción con creencia con sinceridad de que no se nos ha acabado la oportunidad de que mientras hay vida hay esperanza y todavía la naval tenemos vida y tiempo

de juego por eso es por lo que yo lo que hago es interpelar a esa unanimidad de los grupos para pedir al gobierno que redoble los esfuerzos y que consigamos salvar hoy también
este obstáculo en la naval eskerrik asko castelo anderea

egun on berriro yo cuando ayer firmamos la unanimidad

y se ve que no la verdad es que la entrada del proponente el señor becerra pues

agradecer al parlamento que si bien físicamente no me ha supuesto mucho he aprendido a cultivar como he dicho antes la paciencia he domesticado mis neuronas yo era alguien de prontos y ahora he aprendido a sosegar en la reflexión no obstante hay veces que estoy a punto

porque esa unanimidad señor becerra de la que usted

supongo que porque como están en la lucha de la izquierda vasca frente a la izquierda abertzale o lo que sea pues seguramente se siente

y además ha dicho que claro que esa unanimidad luego apareció el ere de extinción

y que eso ha cambiado todo cuando usted firmó

ya lo sabía podría haber dicho oiga vamos a meter algo más no es decir usted siempre juega con

intentar diseñar su argumentario pero usted y todos sabíamos el ere de extinción antes de firmar porque lo firmamos a las dos de la tarde más o menos es decir vamos a andar

con cuidado y luego cuando yo he hecho la reflexión sobre si la naval sí y por qué otras no

podemos hacer la ponencia de ezkerraldea y decir que ezkerraldea está mal y eso es objetivo

es fundamental y por tanto se requiere un tratamiento especial pero a lo mejor si se hiciera un estudio en azpeitia saldría que xey también es estratégico en azpeitia o

es decir que por lo menos hay que hacer una reflexión de por qué aquí sí y aquí no habrá que explicar a la sociedad

es lo único que he dicho cuando uno entra en publificar sin más que es lo que usted ha dicho señor becerra lo ha dicho insistentemente y está

norte un artículo suyo en el que habla de recuperar control público

menos del cincuenta por ciento no es publificar no es control público simplemente para que lo sepa y por otro lado

en acompañar sigo reivindicando a veces los acompañamientos triunfan y nadie alaba en que

a veces no terminan inicialmente bien y encima se le acusa de esperarle a godot esperarle a no sé quién y de estar

cómo ha dicho dubitativo una serie de calificativos dubitativos

señor casanova que hace un año presentaron una pnl nos dieron el coñazo para que fuera de urgencia

eso sí que es dubitativo eso es dubitativo entonces que cada uno puede sacar lo que quiera yo simplemente creo que el gobierno

lo hará bien que está peleando para que haya un socio y que cuando haya un socio pues habrá que analizar qué es lo que se puede hacer porque

los socios que ahora han estado que usted ha hablado de que ganaron cincuenta millónes

los mismos socios ganaron cincuenta millónes y luego perdieron no sé cuántos los mismos los mismos socios los mismos socios

se pasó de una cosa a otra habrá que analizarlo y si usted está pidiendo compromiso a los demás yo voy a aprovechar que usted está en una situación privilegiada que acaba de cerrar un acuerdo presupuestario con el gobierno de sánchez en madrid

que publifique la naval que pide con capital o que le haga más carga de trabajo ya que van a conseguir subir el salario mínimo y no sé cuántas cosas esto es una cosa pequeña comparado con eso háganlo si tienen ese compromiso

buenos días gracias señora presidenta señorías
mesedez isiltasuna hace muchísimos años que el turismo supone y

con el ánimo de poner en valor y hacer visible los recursos turísticos que tenemos ya en su día se declaró la fiesta de interés turístico es en la transición cuando se modifica esta estructura

hacen que las denominaciones honoríficas se modifiquen y de ahí viene la fiesta de interés turístico nacional la fiesta de interés turístico internacional y la fiesta de interés

y así hemos estado hasta el año ochenta y siete que sale una orden para declarar estas fiestas de interés y es en el dos mil seis cuando

y además de muchos requisitos como son el que tengan una antigüedad que tengan una continuidad en el tiempo que tenga arraigo la fiesta en la actualidad y que cuente con una

además que supongan manifestación de valores culturales y de tradición popular

importancia como atractivo turístico se declara o se puede declarar como fiesta de interés turístico nacional si previamente ha sido declarada fiesta de interés turístico regional esta es la novedad y

han ido regulando la fiesta de interés turístico regional para

ayuntamientos consejos de gobierno el propio gobierno

lo pueda impulsar con el fin de que pueda tener aquellos que deseen relevancia a nivel nacional o a nivel internacional pero en esta comunidad autónoma esto no lo hemos hecho somos la única comunidad autónoma que después de doce años de tener la posibilidad de regular las fiestas de interés turístico regional no lo hemos hecho

según la ley orgánica de mil novecientos setenta y nueve de dieciocho de diciembre del estatuto de autonomía del país vasco

tenemos competencia exclusiva en esta materia en el año dos mil dieciséis

la ley de turismo que dice que la administración turística de euskadi impulsará la especialización de la oferta turística de euskadi promocionará los recursos turísticos e impulsará el turismo como un sector estratégico y euskadi como destino turístico me parece muy importante

de primer orden que debe contribuir eficazmente a reducir la desigualdad y a promover sociedades pacíficas e inclusivas y dice además que

que tuvo lugar en euskadi que en las políticas de turismo sostenible

de las comunidades locales en este momento la comunidad autónoma del país vasco está en inferioridad de condiciones que el resto de comunidades autónomas españa para poder promover aquel que así lo estime oportuno sus fiestas como fiestas de interés nacional o fiestas de interés internacional me dirán ustedes

no lo sé a nosotros nos llegó desde algún ayuntamiento esta deficiencia y nos lo trasladó y como nos parece oportuno que generemos oportunidades o iguales oportunidades a todo aquel que lo considere oportuno nos parece que

obligación o por lo menos tenemos la responsabilidad de regular esta fiesta de interés turístico regional para propiciar igualdad de oportunidades

nosotros creemos que regular la declaración de fiesta de interés turístico de españa en ningún caso resta creemos que es una figura que nos permite poner en valor como decía nuestras fiestas en euskadi y también en el resto del mundo

y a nivel mundial yo creo que se entiende fácil que es oportuno el regular

de interés regional presentamos la iniciativa en esta cámara se presentaron una enmienda porque creo que la de eh bildu no entró

la hemos visto también pero nos parece que tiene poco que ver con la iniciativa que nosotros presentamos tiene más bien que ver con el patrimonio y el proyecto de ley que se está tramitando en esta cámara por lo tanto entendemos que

junto con la enmienda que ha presentado el gobierno hemos llegado a un acuerdo en el que

de sus órganos de coordinación interdepartamental y de los objetivos del plan estratégico de turismo

el interés que pueda aportar la distinción honorífica para aquellas manifestaciones festivas que tengan una potencialidad turística en el país vasco y que fruto de este análisis se regule el procedimiento para declarar fiesta de interés turístico de euskadi

unos valores culturales un notorio enraizamiento en la tradición popular de euskadi y una especial importancia como atractivo turístico decir que efectivamente yo

allá donde los haya puede venir del propio departamento y lo importante es que

apuesta que se puede hacer desde un ámbito local sea la comunidad autónoma la que reconozca

si así lo estiman oportuno transite por unas oportunidades que le da esta declaración creo que es bastante sencilla la iniciativa de entender y creemos que es oportuno hacerlo por lo tanto es por lo que la traemos a esta cámara y porque esperamos que cuente con el

los grupos muchas gracias eskerrik asko lopez de ocariz andrea zuzenketak

señorías la pretensión de la proponente con su iniciativa es la de regular en euskadi la declaración de fiesta de interés turístico para posibilitar además si fuera de interés de los solicitantes cumpliendo además las condiciones establecidas por la orden ministerial

y partimos del hecho de que la declaración de fiesta de interés turístico es una denominación honorifica entre mil novecientos sesenta y cinco y mil novecientos ochenta y siete se otorgaba

para fomentar principalmente el turismo y sobre todo el turismo extranjero

un fenómeno económico en españa esta denominación lo decía antes la proponente se creó en mil novecientos sesenta y cuatro

según la importancia del evento podía ser internacional nacional o simplemente de interés turístico y una segunda restructuración la de mil novecientos ochenta y siete que tuvo que ver expresamente con la determinación del mapa autonómico de españa y con la adquisición competencial en materia de turismo

de las comunidades autónomas es cuando se crea entonces la declaración de fiesta de interés turístico

por la orden de tres de mayo de dos mil seis en la que su artículo dos punto tres establece que para ser declarada fiesta de interés turístico nacional

declarada como fiesta de interés turístico por parte de la comunidad autónoma en el momento de la solicitud y haber estado

al menos durante los cinco años inmediatamente anteriores y asimismo el artículo

se refiere a que la fiesta cuya declaración de interés turístico internacional se solicite deberá en el momento de la solicitud haber sido declarada de interés turístico

anteriores inmediatos y por tanto la declaración de una fiesta como de interés turístico en euskadi y también su regulación pertenece en exclusiva al ámbito competencial de la comunidad autónoma por lo tanto competencia del gobierno vasco y en este sentido la propia ley de turismo de euskadi en dos mil dieciséis

que el turismo es una actividad económica de primer orden que debe contribuir eficazmente a reducir la desigualdad y a promover sociedades pacíficas e inclusivas

que el turismo preservará los recursos actuales de cara a las generaciones futuras asegurando la protección y la integridad de nuestro patrimonio común e inmaterial y se dice también que el turismo además de sus inherentes valores de orden cultural se configura como una actividad del sector servicios que genera

económicos y ante esta iniciativa los socialistas vascos junto con el grupo nacionalistas vascos propusimos una enmienda que planteaba dos cosas tener en cuenta por un lado

y también por otro lado los objetivos del plan estratégico de turismo comercio y consumo dos mil diecisiete dos mil veinte

si resultara interesante la regulación de un procedimiento que realizase digamos que regulase la declaración de fiesta de interés turístico aquellas fiestas o acontecimientos que supusieran

enraizamiento en la tradición popular de euskadi y que tuviese una especial importancia como atractivo turístico y hacíamos ese planteamiento de análisis de la iniciativa en ese marco

con las líneas y con los objetivos que el gobierno vasco se ha fijado para el ámbito turístico tanto a nivel territorial en euskadi como a nivel estatal y a nivel internacional para darle en su caso una mayor proyección y peso al interés de una declaración que exclusivamente a día de hoy tiene un interés honorífico y porque tener en cuenta la estrategia de internacionalización basque country porque el principal objetivo del ámbito turístico para

es el desarrollo de la visión del sistema turístico vasco coincidente en objetivos generales con los que persigue la estrategia euskadi

trasciende el enfoque institucional empresarial cultural o turístico que tradicionalmente había liderado la actividad exterior de los territorios

a todos los departamentos del gobierno en la cuestión de la internacionalización y porque hace partícipe de esa estrategia a la sociedad en su conjunto y a los diferentes agentes económicos y sociales tanto públicos como privados

pretendemos impulsar aquellos elementos que singularizan nuestro destino como elemento de referencia básica

es uno de los diez objetivos que deben tenerse en cuenta para conseguir un objetivo estratégico principal el del fortalecimiento de la internacionalización de euskadi y además la proyección de euskadi basque country es uno de los pilares sobre los que asentar la reactivación y la creación de empleo en euskadi y por qué proponemos además el análisis de esta iniciativa también dentro del marco del plan estratégico de turismo comercio y consumo pues bien porque los objetivos para el desarrollo del turismo vasco en ese horizonte dos mil veinte están plasmados en las líneas estratégicas del plan director de turismo

común acuerdo con la estrategia basque country dos mil veinte la gobernanza turística de euskadi

de la cultura y las tradiciones se potenciara además que el efecto directo del turismo y su impacto en el resto de la economía

y asimismo el turismo en euskadi en su desarrollo será socialmente sostenible para asegurar que su evolución sea compatible con la capacidad

riqueza los nuevos retos del turismo tienen una gran importancia económica social y política en euskadi y la estrategia

impulsada desde las instituciones con acciones de carácter público y privado que aporten un alto valor

aquellos que visitan euskadi que nos visitan desarrollando a su vez la marca

asociada al turismo y el gobierno vasco tal y como tiene planteado en su programa de gobierno y en el plan estratégico de turismo comercio y consumo

en el mercado autonómico estatal e internacional los atractivos de las fiestas y acontecimientos vascos que impliquen una apuesta por los valores culturales o sociales que tienen

y respecto a la enmienda que no ha podido ser admitida por cuestión de tiempo de bildu

creemos que su propuesta estaba asumida en lo que es la enmienda que hemos presentado

vascos porque su propuesta de recoger la categoría de eventos festivos entre las categorías del patrimonio inmaterial que forman el patrimonio cultural vasco de la comunidad autónoma vasca

en lo que es el proyecto de ley de patrimonio cultural vasco en su artículo once expresamente así lo confirma

vascos y los del grupo nacionalistas vascos hemos planteado diversas enmiendas a ese proyecto de ley

que hay más en las que no solamente mantenemos ese artículo once en el cual están los actos festivos como patrimonio

de ese proyecto de ley es una salvaguarda una protección desde el ámbito jurídico del patrimonio cultural vasco también comprendido el patrimonio inmaterial por lo tanto aquellos actos festivos que son valores culturales

o costumbres de euskadi también se ven protegidos también forman parte de lo que es la enmienda que habíamos planteado el grupo socialistas vascos y el grupo nacionalistas vascos y que también se recoge en la enmienda que hemos transado con el grupo popular

a ambos lados del pirineo lo cual no es de extrañar ya que

hay más manifestaciones folclóricas que en toda la europa occidental en la que nos encontramos y muchas de esas manifestaciones se dan en el entorno de nuestras fiestas es en muchas ocasiones en el entorno de nuestras fiestas donde se desarrolla nuestra lengua nuestro folclore nuestras danzas nuestras canciones

nuestros instrumentos autóctonos nuestro deporte rural es en nuestras fiestas cuando se llenan nuestros txokos y sociedades porque también la gastronomía es parte importante en nuestra cultura

celebramos absolutamente todo las batallas que ganamos las que perdimos tenemos fiestas religiosas paganas fiestas inmemoriales fiestas inmemoriales que lo son desde antes de ayer

tenemos hasta fiestas políticas hoy se nos plantea la conveniencia o no de articular un reglamento para poder declarar nuestras fiestas las que estimemos como fiestas de interés turístico de euskadi

tampoco en el capítulo quinto en el que se regula el patrimonio etnográfico sí están reconocidas como patrimonio cultural inmaterial la ley para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial del dos mil quince del estado

en el proyecto de ley de patrimonio cultural que se está trabajando en este mismo parlamento

como patrimonio cultural de interés turístico la declaración de interés turístico debiera estar abierto en su caso al conjunto de los bienes que constituyen el patrimonio cultural inmuebles muebles

las cuevas de ekain el puente colgante o la catedral de santa maría por poner solo unos ejemplos no podrían ser también de interés turístico

los bienes que por su antigüedad atractivo singularidad etcétera quieran destacarse en la oferta de turismo cultural de euskadi de ahí que hayamos llegado a una transacción con el proponente

si eso que no se ha visto necesario o útil en los últimos cuarenta años pueda serlo hoy y si esto encaja con los retos estratégicos y los objetivos de los que el propio departamento se dotó

dos mil diecisiete dos mil veinte y de esta manera impulsar aquellos elementos que singularizan nuestro destino como elemento de referencia básica para el posicionamiento de la marca turística

a todo esto nos enfrentamos a estos objetivos evitando la masificación y la estacionalización acertando en el target que queremos que venga a compartir con nosotros también nuestras costumbres nuestras fiestas y nuestro carácter

a la hora de atraer visitantes extranjeros y además este reglamento

y puesta en marcha deberá coincidir y compartir objetivos con la estrategia

que liderada por el lehendakari en su primer párrafo dice los constantes cambios geopolíticos sociales y económicos que se producen en el mundo globalizado afectan más que nunca a euskadi y a la sociedad vasca la internacionalización se ha convertido en un reto de país porque permite afrontar los desafíos globales y capturar nuevas oportunidades preservar nuestra identidad

objetivos como potenciar además que el efecto directo del turismo y su impacto en el resto de la economía contribuyan a la generación de bienestar en la sociedad vasca asimismo el turismo en euskadi en su desarrollo será social y medioambientalmente sostenible para asegurar que su evolución sea compatible

y la capacidad de continuar generando riqueza con una planificación turística integral que ayude a la distribución de flujos por todo el territorio y un nuevo modelo de gestión y gobernanza en euskadi para gestionar los nuevos retos del turismo

económica social y política en definitiva

en el monumento a los fueros de pamplona gu euskaldunok

hoy la señora lópez de ocariz nos ha traído a esta cámara

la declaración de fiesta de interés turístico en la iniciativa registrada inicialmente por el grupo popular se instaba al gobierno vasco a otorgar esta denominación a aquellas fiestas o acontecimientos que supongan manifestaciones de valores culturales

y que tengan especial relevancia como atractivo turístico hagamos un poquito de memoria como así han hecho

y estoy convencida además de que todas las parlamentarias de esta cámara están expectantes ante el debate de este segundo punto

por ello hay que recordar que la categoría de fiesta de interés turístico fue una denominación honorífica otorgada a festejos acontecimientos que se celebraban en el estado español entre mil novecientos sesenta y cinco

y que ofrecían interés real desde el punto de vista turístico para fomentar el turismo que en aquella década supuso un fenómeno económico esta denominación honorífica fue creada

en mil novecientos sesenta y cuatro pero en esta ciudad es más conocido como responsable de los asesinatos del tres de marzo

han relatado las anteriores intervinientes se produjo una estructuración al asumir las comunidades autónomas más competencias y entre ellas las del sector turístico el ministerio de transporte turismo y comunicaciones decidió que las fiestas de interés turístico pasaran a ser de ámbito territorial

por lo que se crearían las declaraciones de fiestas de interés turístico a nivel autonómico y les voy a ahorrar las categorías que ya han relatado además muy detalladamente tanto la señora corcuera como la señora lópez de ocariz en la actualidad tal y como

el país vasco es la única comunidad autónoma que no regula este procedimiento

y sé que llegados a este punto del relato están ustedes en un sin vivir

hemos reconocido públicamente en multitud de ocasiones todos los aspectos positivos que aporta a la sociedad el turismo que tampoco puede

turístico pero no podemos centrar el modelo turístico de euskadi en el monocultivo y en el monopolio más aun cuando este se ve favorecido por acción y u omisión por parte de quienes mandan más preocupados por atender las exigencias de los lobbies que las necesidades y derechos de la población

a una fiesta o acontecimiento vinculado a las características culturales

esta denominación deberá repercutir en las economías locales y no suponer ningún contratiempo para las vecinas que habitan en ese lugar o en ese municipio es decir que no sirva para justificar el reparto a dedo de subvenciones nominativas

que no sirva para que permítanme la expresión monten cuatro su chiringuito y sí para diversificar y ampliar la oferta turística en euskadi y no concentrar el turismo

lugares que se establezcan bien los criterios que la comida popular de cualquier pueblo no sea declarada de interés turístico y que se dé importancia a aquellos actos

la identidad de una comunidad sus expresiones y las que remarcan nuestra riqueza cultural y nuestra diversidad desde elkarrekin podemos ya hemos señalado

pero que cuando fomenta flujos turísticos de manera descontrolada tiene un impacto negativo en la sociedad vasca el incremento de la tasa de beneficio no lo olvidemos es el dogma de todo negocio capitalista dogma que en el caso que nos ocupa

el territorio cuyas consecuencias sociales culturales y medioambientales han sido objeto de análisis académicos y protestas sociales durante décadas consecuencias que

con un nuevo maná económico del que brotará progreso y felicidad para todas

que la tercerización de la economía que ello implica es una buena muestra de su sumisión a los poderes que realmente diseñan el futuro de los países en europa

es sagrado así funciona la lógica neoliberal no hay que ser un lince para concluir que fiar el futuro al incremento perpetuo y descontrolado del número de turistas es insostenible

como ya hemos dicho en multitud de ocasiones que se promueva un modelo de gestión turística que contribuya eficazmente al mantenimiento y protección del patrimonio cultural y natural de los destinos turísticos vascos que el objetivo sea siempre el desarrollo sostenible y se promueva la autenticidad sociocultural de cada destino y comunidad que se establezcan relaciones

y con productoras y artesanas locales de los diferentes destinos y ahora ustedes nos presentan la siguiente enmienda de transacción que por ahorrarles tiempo no les voy a leer porque creo que ya la han leído tres veces

sí que habría que indicar que hemos pasado de instar al gobierno vasco a regular a estudiar el interés

muy del gobierno ya estamos acostumbradas desgraciadamente a que en las iniciativas realizadas y apoyadas por el gobierno se utilicen estas expresiones carentes

la verdad es que no tenemos muy claro que la regularización de esta denominación viendo muchos ejemplos que ya existen repercuta de manera positiva en la ciudadanía vasca

y por lo expuesto anteriormente nuestro grupo parlamentario se abstendrá y seguiremos trabajando por un turismo en euskadi inclusivo e integrador que no excluya a nadie

a todas las economías y bolsillos y en eso señoras parlamentarias es en lo que tendríamos que centrar los debates del departamento que el señor retortillo lidera eskerrik asko

inguruko jaiak montatzen zirela y es que en las ediciones más concurridas de la magdalena como decía se han acercado a elantxobe en un pueblo de algo más de trescientos sesenta habitantes hasta veinte mil y treinta mil personas en sus ediciones más participadas

si se quiere sin tener una estrategia internacionalización expresa para ello una

y no hace tantos años era una celebración reducida en cuanto al número de personas que se juntaban los vecinos de la villa cuando al puerto llegaban los barcos procedentes de bermeo creo que todos y todas conocemos de qué va y el ejemplo de elantxobe como decía puede ser un tanto extremo porque eso no ocurre evidentemente en todos

y el mantenimiento de tradiciones populares y la vivencia que tenemos las personas de las mismas y ustedes vienen hoy aquí con un acuerdo sobre el interés del punto de vista turístico de estas festividades

las fiestas de nuestros pueblos villas ciudades etcétera es decir las fiestas populares de la gente como medio porque al fin y al cabo es lo que ustedes están planteando

estas fiestas populares estas fiestas de la gente estos espacios

qué potencial turístico pueden tener y qué aportación pueden tener a la industria del turismo y sobre todo y ante todo en términos económicos

euskadi basque country dos mil veinte a la estrategia de internacionalización y de consumo y

saber cuál es el sujeto de la propia oración pero realmente el patrimonio no está en el centro y la preservación y la

horrela izan behar duela eta bat egiten dugula poner y anteponer el interés de salvaguarda y de puesta en valor de dicho patrimonio por delante

gracias al grupo nacionalistas vascos y a nacionalistas vascos y también a los demás grupos por la bueno por considerar esta iniciativa por lo menos

y yo creo que tiene más fondo del que en algunos momentos se le atribuye decía el señor estarrona y comparto yo con usted que tanto la ley de patrimonio el proyecto de ley de patrimonio que está tramitando junto con esta iniciativa desde nuestro punto de vista son complementarias son complementarias porque usted lo ve desde un aspecto que donde pueden entrar determinadas fiestas y valores culturales y también bueno

puede caber la fiesta del vino o la fiesta del queso

que hay que valorarlo efectivamente yo no voy a decir si tiene que estar en el amparo de la ley de patrimonio o en otro amparo de otra ley sería un decreto a desarrollar y que nosotros desde luego no nos oponemos que tenga distintos perfiles porque creo que los tienen las fiestas

festividades que podemos poner en valor pues también se unen valores de patrimonio y todo habrá que valorarlo claro que sí pero nosotros creemos que

tenemos que jugar todos con las mismas oportunidades y de eso se trata en esta iniciativa de que tengamos regulado igual que nuestros vecinos de cantabria navarra o la rioja

culturales del patrimonio efectivamente pero también de las fiestas y si uno se va a las declaraciones de fiestas de interés nacional pues salen las semanas santas de

de casi toda españa muchas fiestas relacionadas con el producto local el marisco el jerte por el cerezo

hay muchos elementos de mucho valor local que se pone

no solo es la fiesta por sí mismo sino el elemento que estamos festejando que también es un valor local por eso hacía yo antes referencia a la declaración

y promocionar lo local desde lo local hacia arriba por lo tanto

me parece que en esto hay que trabajar en esta línea porque es la que suma no resta

proyecto de ley que se está tramitando y a las enmiendas que se están planteando nosotros creemos que esto suma que es un complemento y por eso creemos que lo debemos de hacer es verdad que no hemos puesto carácter de urgencia no

lo que hay que hacer es dar a conocer a aquellos ayuntamientos la posibilidad

fiestas bajo este amparo y si lo desean bien y si no tienen la oportunidad para aquel que lo quiera promover o el propio departamento lo puede promover a un ayuntamiento oye yo creo que tienes unos valores

y que sería bueno creo que es interesante valorarlo y por eso pues es la iniciativa que nosotros hemos planteado y en cuanto a que decía la señora la portavoz del grupo podemos me decía

que el turismo es mucho más claro que es mucho más el turismo y de hecho en la documentación que hay que aportar y que yo me he fijado en el decreto que regula

el origen la fecha de celebración la descripción de los actos la fiesta

o el acontecimiento de que se trate infraestructuras turísticas

hay un elenco de requisitos que es no voy a llevar a un espacio

que no puede absorber yo creo que sí se está mirando desde una óptica sostenible no está mal recordarlo no está mal recordarlo yo creo que hay que recordarlo en cada actuación

olvidar y me parece bien que lo recuerde pero yo que he cogido como modelo el decreto de navarra pues me parece que siendo del dos mil diez que no es del dos mil dieciocho me parece que recoge ya apunta a una manera de actuar respetuosa con el entorno

que efectivamente no pueden absorber determinada promoción nada más muchas gracias

gracias presidenta y brevemente para señalar en primer lugar que puedo entender aunque no compartir todas las

como el grupo euskal herria bildu yo entiendo que a veces a uno le puede costar el llegar

pero en esta cuestión que es verdad que podía parecer

un par de vueltas al asunto y al menos a los grupos

en concreto más específicamente cuando analizamos esta cuestión

tenía que ser algo más que una mera declaración o una regulación de una declaración que tuviese un título

porque a las cosas hay que darles un sentido y un contenido y una mayor proyección de ahí que marcásemos esta cuestión

comercio y consumo porque son dos ámbitos que

y se produce esa regulación de la declaración de fiesta de interés turístico se puede llegar al último nivel que es el de internacionalización pero con un carácter no exclusivamente

de lograr objetivos y en este caso que el turismo que tiene objetivos bien claros y bien definidos que la estrategia internacionalización basque country también tiene sus objetivos sus líneas estratégicas y sus líneas de actuación sean ese marco

y donde enmarcar una fiesta y el carácter de fiesta interés turístico nos parece muy oportuno porque es verdad que el turismo está adquiriendo un peso específico en euskadi es verdad que todos intentamos que no haya esa masificación y que se prioricen valores culturales valores de enraizamiento de nuestras fiestas digamos de lo que es el turismo

evidentemente lo que proponemos es un modelo turístico sostenible desde el primer día desde que el consejero expuso en comisión cuáles eran las líneas estratégicas de su departamento nadie quiere un modelo turístico insostenible en euskadi nadie nadie está trabajando para eso al contrario se están poniendo medios y acciones

entendemos que era necesario darle un marco un contenido a esa posible regulación de la declaración de fiesta de interés turístico y yo creo que entre todos entre la proponente y los grupos que sustentamos al gobierno hemos conseguido

ese marco donde se analice realmente el interés y si son compatibles esa regulación con los objetivos que nos hemos propuesto en ese marco de internacionalización y también en ese marco turístico aprovechando nuestras fiestas por eso quería agradecer a la proponente su iniciativa que en un principio parecía muy simple pero que luego es verdad que ha dado

también a trabajar a los distintos departamentos del gobierno

intervienen otros departamentos a través de la estrategia de internacionalización

reiteramos nuestro interés en la necesidad de enmarcar esta propuesta

planes estratégicos en esa estrategia de internacionalización y en el plan

yo leí su enmienda porque luego llegué tarde a ver que no estaba admitida

y los actos festivos tienen otros valores

festivo y al menos exponen y proyectan otra serie de valores

bien regionales y creo que hay que darle un contenido como patrimonio inmaterial

once no entendía su enmienda y como además ese proyecto de ley lo que pretende es darle un ámbito jurídico una regulación jurídica a la tutela a la salvaguarda del patrimonio inmaterial cultural vasco

esa enmienda que hemos transado está esa salvaguarda esa tutela y esa protección jurídica que yo comparto con usted en que las fiestas pues efectivamente cada vez se masifican más pero son determinados y contados días en los que tenemos que soportar a veces pero que no tienen en muchas ocasiones que ver con el turismo porque tampoco el ámbito a veces nos da para todas las fiestas y este sería el caso no todas las fiestas en euskadi podrían tener en su momento

todas las fiestas todas y cada una de las fiestas que existen en nuestra comunidad nada más y muchas gracias eskerrik asko

el turismo en euskadi en su desarrollo será social y medioambientalmente sostenible para asegurar que su evolución sea compatible con la preservación de la calidad de vida de la ciudadanía

si estas circunstancias no se dan lo lógico es que el departamento de turismo no entre a esa calificación

no es que regulen directamente esto que se pedía en la proposición inicial sino que estudien si realmente pueden regularlo atendiendo a lo que dicen tanto

a mí me da la sensación de que declarar únicamente las fiestas como bien turístico se queda corto yo creo que tendríamos que tener en cuenta también el conjunto de los bienes culturales

o hay manifestaciones digamos de tipo festivo de tipo folclórico que no se entienden sin su entorno más cercano por lo tanto yo creo que todo eso debería estar guardado o salvaguardado

en esta transaccional que hemos planteado en cualquier caso

inauterietara por cierto mucho más divertidos en mi opinión

claro sabes qué es lo que pasa señor grajales es que el término sostenibilidad está muy prostituido porque para lo que ustedes es sostenible para nosotros como grandes infraestructuras que se están construyendo en este país no es tan sostenible por lo tanto hablar de sostenibilidad y decir que con eso está asegurado

el carácter de nuestras fiestas popular de alguna manera pues

a mí me parece que para nada puede estarlo y menos con las líneas que me ha leído usted de esa estrategia de turismo euskadi basque country señora lópez de ocariz es verdad

pero también es complementario por ejemplo una empresa que tiene un producto para su venta y luego el departamento de marketing y ventas y lo que no puede ser es que primero pongamos en marcha el departamento de marketing y ventas

y es lo que ustedes hoy están haciendo aquí es lo que están haciendo aquí complementarios sí pero primero vamos a hablar sobre el producto vamos a ver qué necesidad tiene ese producto y vamos a ver si realmente tienen un potencial turístico y si además

mantenga sus elementos valiosos originarios

desde un punto de vista turístico y señora corcuera para nada me cuesta llegar a un acuerdo a euskal herria bildu no nos cuesta llegar a acuerdos no tenemos ningún problema en acordar

solo acordamos cuando consideramos que es positivo y a nosotros esto lo que hoy se está solicitando al gobierno vasco nos parece un error y nos parece un error de bulto y por eso no vamos a apoyar dicha enmienda transaccional ni el acuerdo que ustedes

han alcanzado porque usted vuelve a decir que no sabe que es lo que no entiendo de la enmienda transicional no se habla de salvaguarda de ese patrimonio no se habla

de lo que puede suponer las fiestas como patrimonio cultural inmaterial para nuestros pueblos ciudades etcétera y sus gentes no se habla no se habla no se recoge ninguna medida es decir se utilizan las fiestas como medio y como potencial

por lo tanto y lo ha vuelto a leer y lo ha vuelto a releer y vuelvo a decir en una oración de diez líneas sin ningún punto pues bueno se me hace muy difícil discernir realmente dónde se pone

creo considerar que no está recogido tal y como usted defiende

el artículo al que usted hace referencia el artículo once se le añade luego en la ley de patrimonio cultural en el capítulo tres del patrimonio cultural inmaterial

recoge en su punto número dos que el régimen de protección de los bienes culturales inmateriales declarados deberá señalar

fomento y difusión que le serán de aplicación es decir antes de que esta ley entre en vigor de la cual hay un acuerdo

antes de que lo recogido y regulado en esta ley sobre la conservación fomento y difusión que le serán de aplicación a dicho patrimonio antes de eso ustedes están solicitando al gobierno vasco

que ponga en marcha un plan para potenciar estas fiestas

pero lo están haciendo y luego en el artículo cincuenta y ocho habla de los mapas de bienes culturales inmateriales que va a ser finalmente los bienes que tiene que realizar para la salvaguarda de los bienes culturales inmateriales y dentro de eso están las tradiciones

de los pueblos y antes de tener ese bien y ese inventario de bienes y de fiestas y de festividades sabiendo que tienen que atender a unos requisitos y sabiendo que su conservación su fomento y su difusión van a estar recogidos antes de tener el inventario de ese bien

son expertos se le insta al gobierno vasco al departamento que ellos bajo su criterio consideren qué festividades pueden tener un potencial turístico siempre anteponiendo los intereses de la industria turística a los intereses de nuestro propio y su singularidad y luego y por último en el sexto punto de este mismo artículo habla y además es que así lo matiza y expresamente y me parece importante remarcarlo

de las comunidades portadoras afectadas en su vertiente no solo económica

fundamentalmente social y cultural y eso es lo que nosotros y por eso es por lo que euskal herria bildu hoy no va a apoyar su enmienda porque antepone los intereses de la industria turística y el turismo y lo que eso puede reportar a la industria del turismo frente a los intereses de la salvaguarda

izan ehun eta hirurogei langile berrietatik bigarren albistea solo el veinticinco por ciento de los nuevos convenios

de igualdad salarial la negociación pública se usa poco aún son menos los que contienen medidas para luchar contra la precariedad laboral femenina ni el veinte por ciento tres el número de mujeres que cobra menos de mil euros duplica

cuatro la discriminación laboral de las mujeres se escapa a la inspección de trabajo en dos mil diecisiete se castigó a ciento treinta y cinco empresas

logra resultados en las empresas españolas noticias del dos mil dieciocho datu eta titular gehiago eman ahalko

la iniciativa que nos propone el grupo eh bildu

de la misma y la conocimos nos pareció una buena iniciativa nos pareció oportuna nos pareció que era una buena idea tal vez no novedosa pero es una buena idea y precisamente porque no es novedosa

podido llegar a un acuerdo mayoritario para que la iniciativa salga adelante porque además pensamos

el conjunto de grupos de la cámara que la iniciativa podía haber salido adelante con las diferentes aportaciones de los diferentes grupos

un par de cuestiones primero para dotar de más contenido a los requisitos que entendemos que tiene que tener un certificado de igualdad para las empresas

que incluyéramos una serie de requisitos por una cuestión fundamental el certificado tiene que servir o nosotros pensamos

tendría un recorrido limitado para establecer una línea de corte entre las empresas es decir para nosotros

lo interesante de la propuesta de tener un certificado de este tipo

signifique una línea de corte entre las empresas que tienen el certificado y las que no la tienen que pensamos que es la principal diferencia que puede añadir con lo que existe actualmente

con el título conocido como entidad colaboradora para la igualdad de mujeres

al que se ha referido la señora etxebarrieta a nosotros también

nos parecía bien estábamos de acuerdo en que si se transaccionaba se partiese

pero yendo más allá de un simple cambio de nombre no se trata de cambiar el título entidad colaboradora por el de certificado si no que se trata de cambiar los contenidos los requisitos y para qué va a servir para que efectivamente pueda suponer

nos parece interesante por lo tanto nosotros incluíamos por un lado una serie de contenidos en concreto a la hora de conseguir el certificado que asegure la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los grupos y categorías profesionales

para combatir la discriminación y la desigualdad en el mundo del trabajo porque son fundamentalmente las mujeres las que suelen tener categorías

y luego desarrollan en su día a día trabajo que corresponde a otras categorías siempre superiores siempre tienen una categoría reconocida en el contrato y en la práctica hacen trabajos de categorías superiores también pasa en el caso de muchos hombres pero fundamentalmente son las mujeres

esta discriminación por supuesto incluíamos que haya igualdad salarial real y añadíamos el tema de la publicidad de las empresas que finalmente queda redactado con que cumpliese el decálogo

una serie de cuestiones que creíamos que eran bueno que se aportasen a los requisitos

a este certificado y luego en segundo lugar matizábamos o añadíamos aunque ya estaba de alguna manera también en la propuesta

algunas de las cuestiones de para qué tiene que servir ese certificado por un lado en el ámbito privado de actuación de las empresas para que sea una herramienta

que puedan utilizar las empresas en su promoción que sea

ese certificado como efectivamente una línea de corte que nosotros veamos esta empresa tiene este certificado esta empresa

de igualdad que exige esta sociedad pero esta empresa que no tiene este certificado no cumple no tiene criterios de igualdad y en concreto

contrataciones con la administración pública donde podemos actuar pues nos parecía

que se incorpore de manera prioritaria como cláusula de igualdad en la contratación pública

y a alguien quizás le pueda parecer exagerado esto yo creo que no lo es y creo que incluso algunos de los grupos que no van a apoyar la transacción a la que hemos llegado eh bildu y elkarrekin podemos

en realidad están de acuerdo con esta cuestión y nos parece muy importante también esto precisamente para establecer esa línea de corte para que las empresas se vean en la obligación de tener este certificado porque esa

no queremos solamente que haya empresas que tengan en su buena voluntad la intención de ser

queremos establecer un certificado que discrimine entre las empresas criterios y las empresas que no cumplen un certificado que sirva para que las empresas que cumplen tengan el visto bueno de la sociedad y de las administraciones públicas

no tengan el visto bueno ni de la sociedad ni de las administraciones públicas y por lo tanto que las empresas que no cumplen tengan dificultades

de cumplir una serie de requisitos y acceder a ese certificado porque nos parece que es la manera más efectiva de luchar

que no podemos dejarlo todo a la buena voluntad de unas y otras empresas porque vemos que en la práctica real habrá quienes sí están dispuestas a abordar la igualdad en el entorno de sus empresas

las prioridades en el ámbito del mundo empresarial fundamentalmente son económicas y de beneficio empresarial bueno

creemos que el grupo más reticente a la última oferta que se estaba haciendo desde el grupo proponente ha sido el partido popular

partido nacionalista vasco y partido socialista no hayan llegado a un acuerdo con en este caso con el grupo proponente y también

por la labor y le voy a dar la razón a la señora etxebarrieta la transacción que va a perder hoy era la transacción

avanzar y en cambio la que se va a aprobar simplemente nos va a permitir

que no vamos a decir que esté mal pero desde luego que es insuficiente y que nosotros pensamos que podíamos haber dado un paso

mucho mayor lamentamos que no salga adelante la iniciativa pensábamos que era realmente una buena iniciativa y lamentamos que no haya podido salir adelante porque pensamos de verdad que partido socialista y partido nacionalista vasco

prácticamente voy a decir de acuerdo con lo que los del grupo de este lado de la cámara

en lo existente actualmente para fomentar la conciliación y conciliación de la vida laboral familiar y personal en el ámbito de las empresas porque

y es una convicción de que para avanzar realmente en la igualdad de oportunidades en una sociedad y que la sociedad sea más justa realmente hay que avanzar en materia de conciliación

que la llevamos como partido y desde luego nos la creemos y por eso nuestras iniciativas van encaminadas precisamente a garantizar esa igualdad de oportunidades y para lo que

es absolutamente imprescindible y le digo lo de avanzar porque si usted que como ha sido así además ha leído bien la propuesta del partido popular reflejada en la enmienda de totalidad presentada nosotros planteamos dos propuestas muy concretas una de ellas

este portal actualmente existe pero es un portal y a tenor de la información que nosotros hemos recabado y que se nos ha hecho llegar

que no es muy conocido y por lo tanto nosotros consideramos

nos lo han dicho que es un portal que está bien pero que no es efectivo realmente para las empresas en materia de conciliación en nuestro primer punto habíamos recogido expresamente que se potencie este portal que ya lo tenemos es decir una herramienta que ya la tenemos configurada pero ponerla realmente

pero como una herramienta efectiva que realmente apoye y acompañe a las empresas en esa labor de asesoramiento en estas materias y fíjese si queríamos avanzar y avanzar significativamente

hablábamos de crear el distintivo euskadi concilia que además esta es una iniciativa que ya trajimos para su debate en pleno a propósito de las propuestas de resolución que se debatieron en el plan de familia

aceptación por parte de los grupos parlamentarios y no creo que esta propuesta difiera mucho en lo que es la propuesta de

haya sido posible llegar a un acuerdo nosotros planteamos la creación de un distintivo euskadi concilia

que implementen medidas que favorezcan y garanticen la igualdad y la conciliación

que ustedes se centran solo en la igualdad sí son cuestiones que están muy unidas pero yo creo que no se nos puede olvidar la palabra conciliación y ustedes en su texto también la han

no es justo señor hernández que diga que otros grupos no hemos querido avanzar porque si usted se ciñe al contenido estricto de la enmienda del partido popular

específico creo que son unos avances significativos finalmente hemos llegado a un acuerdo con el

avanzar sí que es cierto que tampoco ha habido un planteamiento de aceptar en su integridad los dos puntos sí uno de ellos

pero entendíamos que aunque había puntos coincidentes de la enmienda de totalidad propuesta por los grupos que apoyan al gobierno con la iniciativa original y la enmienda presentada con podemos pues era más acertada la enmienda de totalidad que ha presentado el gobierno creemos que se adapta más a lo que nosotros tenemos

de la conciliación real pero no con hacer brindis al sol que pueden quedar muy bonitos en una tribuna sino con cuestiones que realmente se puedan llevar a la práctica

cuestiones que signifiquen compromisos pero compromisos en primer lugar para las administraciones públicas por eso le vuelvo a recordar es decir hay herramientas también actualmente tenemos

no es un instrumento de referencia para las empresas a la hora de buscar asesoramiento en materia de igualdad por lo tanto creo que está bien avanzar hay que proponer cosas nuevas pero también hay que proponer cosas

y también hay que tratar de mejorar los instrumentos que ya tenemos encima de la mesa que realmente pueden ser absolutamente oportunos y adecuados para el tema que nos ocupa y luego creo que es una cuestión que les se les ha olvidado a ustedes

la enmienda suscrita y en las propuestas presentadas que yo creo que el tratamiento y es una cuestión que también se nos ha hecho llegar a nosotros

es la brecha existente entre las propias empresas yo creo que no podemos hablar y no podemos dirigir las mismas medidas y la misma exigencia entre comillas

empresas grandes que tienen más facilidades de implantar medidas de conciliación y espacios concretos para establecer por ejemplo una guardería

a empresas que son pequeñas pymes que por cierto es la mayoría del tejido empresarial que tenemos en euskadi creo que esa distinción

implantar medidas es absolutamente necesario tenerlo en cuenta

en esta ocasión ha sido así pero bueno hemos estado cerca y creo que tampoco se puede descalificar las propuestas de otros grupos porque realmente

en materia de conciliación de igualdad pero con propuestas concretas y sobre todo con propuestas de mejora de lo que actualmente tenemos e implantar también ese sello concilia que realmente no creo que difiera mucho

difiera mucho de su certificado lo que es el objetivo de establecer un sello pero sí claro en el contenido del sello y el como ustedes lo quieren exigir a las empresas quiero decir también que aquí el camino de implantación del sello es bastante distinto

que tiene el partido popular y obviamente yo respeto el suyo pero también espero que ustedes respeten el mío por lo tanto hemos llegado a un acuerdo de transacción que

de totalidad del partido nacionalista vasco recogidos íntegramente nos parece que hay que seguir prestando ese apoyo a las empresas

ayudar a las empresas a realizar los diagnósticos y planes para la igualdad y también

para la conciliación y dichos planes de igualdad y sobre todo también y vuelvo aquí a incidir en el tema de la distinta tipología de las empresas que tenemos en euskadi y que hay que recordar que el ochenta por ciento si no recuerdo mal son pymes y son pequeñas empresas pequeños negocios autónomos

y por otra parte tenemos ya la entidad colaboradora para la igualdad de mujeres y hombres que está regulada en el real decreto once barra dos mil catorce para la igualdad de mujeres y hombres

y por lo tanto que si es un instrumento útil y hay cuestiones que pueden mejorarse en relación a este instrumento pues creo

es incidir en un instrumento que ya tenemos con propuestas de mejora concretas y por lo tanto son los dos párrafos que ya hemos entendido que están bien de la enmienda

totalidad del pnv y el partido socialista que no proponían tampoco ningún instrumento más pero sí proponían avanzar en los instrumentos que ya tenemos y por otra parte pues se nos recoge la propuesta del portal concilia que como ya he dicho al principio de mi intervención

sea una herramienta efectiva que entendemos que ahora no lo es una herramienta realmente útil para las empresas en materia de apoyo y acompañamiento y en materia de conciliación e igualdad

a todos los grupos porque creo que ha habido un ánimo de llegar a un acuerdo pero ha habido diferencias que no hemos podido subsanar pues especialmente a los grupos del gobierno con los que ha sido posible llegar a este acuerdo besterik gabe eskerrik asko

efectivamente podíamos haber llegado a un acuerdo y la verdad que ojalá hubiéramos sido capaces de haber podido firmar los cinco grupos el mismo texto porque creo que

en esta ocasión ha impedido la unanimidad en esta proposición no de ley que desde luego el partido socialista comparte en la necesidad de ese certificado de igualdad para las empresas y yo creo que

avala donde estamos cada uno y la ideología que cada uno defiende lo que todos tenemos claro la historia que unos tenemos y las que tienen otros

y hoy a través de la proposición no de ley del grupo parlamentario eh bildu discutimos la igualdad en el ámbito de la empresa la igualdad entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo a la formación

también es un principio fundamental que no solo hablamos en el país vasco o no solo se habla en el congreso de los diputados sino que está plasmado en la unión europea

y que ha sido desarrollado también en nuestro ordenamiento jurídico

para la igualdad efectiva de mujeres y hombres una ley que desarrolló el gobierno de rodríguez zapatero a pesar de las obligaciones legales y de los avances alcanzados

en los últimos años la experiencia demuestra las dificultades que las mujeres encontramos para alcanzar la igualdad efectiva y real en los diferentes ámbitos y especialmente en el laboral

ya preveía en su artículo cincuenta la creación de un distintivo empresarial en materia de igualdad para aquellas empresas que destaquen por la aplicación de políticas de igualdad entre hombres y mujeres

en los modelos de organización y en otros ámbitos como los servicios productos y publicidad de las empresas por lo tanto como decía el señor hernández no es una iniciativa novedosa pero es verdad que es importante que aquello que se ha aprobado ya en españa hace algunos años podamos trasponerlo a la política y al día a día de la política vasca

este decreto desarrollaba reglamentariamente la denominación del distintivo de igualdad el procedimiento y las condiciones para su concesión

y las condiciones de difusión institucional de las empresas que lo obtengan y de la política de igualdad aplicadas por ellas establecería los procedimientos de control sobre el mantenimiento de estas condiciones para justificar la concesión o la retirada del mismo en caso de incumplimiento de aquellas por parte de la empresa entre los aspectos más relevantes se encuentra la participación equilibrada entre mujeres y hombres en los ámbitos de toma de decisión

el establecimiento de criterios sistemas de remuneración y clasificación profesional actualizados

se incluyen las actuaciones tendentes a facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral y profesional de todas las personas estableciendo objetivos generales articulando medidas flexibles que permitan su adaptación a la diversidad de necesidades situaciones y carencias que se puedan presentar en

así como la adopción de planes de igualdad y la publicidad no sexista de los servicios o productos de la empresa entendemos que se trata de una marca de excelencia en igualdad

a aquellas empresas comprometidas con la igualdad y que destaquen por la aplicación de políticas de igualdad de trato y de oportunidades en las condiciones de trabajo porque a pesar de que la participación de la mujer en la economía es cada vez mayor y el número de mujeres en puestos de alta responsabilidad no ha dejado de crecer en los últimos años

a pesar de que el número de graduadas en educación supera en los últimos años el sesenta por ciento de las personas que cada año se licencian en nuestras universidades

el grupo eh bildu se menciona la brecha salarial y algunas de las consecuencias que esta brecha provoca se ha analizado que las mujeres necesitan trabajar cincuenta y dos días más al año

y desde luego entendemos que es una de las asignaturas pendientes que desde el mundo de la empresa debiera empezarse a trabajar

entendemos que el gobierno vasco lo tiene en su agenda política y alguno de los puntos

seguramente será una de las medidas que el gobierno ponga en marcha cuando se trate el tema de la brecha salarial

el psoe presentó en el congreso de los diputados una proposición de ley para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y en la ocupación en ese proyecto entre otras cosas se recogía que las empresas que no cumplan se exponían a sanciones

esa ley a pesar de las buenas intenciones a los derechos también obliga y tenía en cuenta como digo las sanciones correspondientes en esta línea ahora ya gobernando el partido socialista obrero español a través de una ley anunciado hace unas semanas por la ministra calvo

por ley a que las mujeres ocupen puestos de liderazgo en las empresas parto de que todos en esta cámara compartimos el deseo de una igualdad real

a los hechos y también a las obligaciones con el mundo de la empresa siempre de la mano de la negociación colectiva y de los sindicatos desde luego contando con esos colectivos como digo que son

también espero que compartamos la necesidad de poner en marcha medidas concretas para luchar contra la brecha salarial para lograr esa meta tan sencilla como es a igual trabajo igual salario

a perseguir buscando la corresponsabilidad evitando lo que hasta el día de hoy viven las mujeres cuando decidimos ser madres sacrificando en muchos casos la vida profesional tres grupos parlamentarios hemos firmado una enmienda que ya ha presentado la señora garrido

ojala hubiéramos sido capaces de haber llegado a una unanimidad porque como digo creo que compartimos la filosofía general y hoy además se ha aprobado una iniciativa en madrid que es la equiparación del permiso de maternidad y de paternidad que creo que también es

de los grupos parlamentarios que no por todos y es una muestra más unida a la propuesta de la ministra calvo que desde luego el partido socialista obrero español y aquí el partido

el objetivo de llegar a la igualdad real en todos los ámbitos que tiene que ver con la vida y desde luego

bildu hoy a debatir que es lo que tiene que ver con las empresas como digo creo que ha sido un problema más de redacción que de otro punto de vista y desde luego

aipamena kontziliazioari eta hasteko eta behin lehenengo puntuan bertan esaten da para la concesión del mismo se tendrá en cuenta entre otros criterios y empieza a nombrar criterios casualidad empieza con que elabore y desarrolle planes de conciliación corresponsable personal familiar y laboral el punto número uno del punto número uno hablamos de conciliación le damos importancia sí no es lo único

este sello no es lo único de lo que habla esta propuesta porque creemos que hablar de igualdad

en este caso de la brecha salarial de la igualdad laboral en contra de la precariedad de las mujeres habla de conciliación pero tiene que hablar de muchas otras cosas y sigue que cuente con planes de igualdad

bueno brindis al sol esan duzu ez dakit nik brindis al sol zer daukan

proposatzen ditugu que se tengan en cuenta entre otros criterios y no vamos a definir nosotras cuáles tienen que ser porque creemos y por eso el segundo punto que el análisis y la readecuación si procede

de los criterios que hoy en día están en el decreto once barra dos mil catorce los tienen que hacer los y las expertas en esta materia y justamente por lo que usted decía porque todas las empresas no son iguales y a todas no se les puede pedir lo mismo habrá otra gente mucho más experta que las que estamos aquí

pero que deberán ser ellas y ellos los que decidan cómo se hace con emakunde con expertas con expertas feministas con los sindicatos y con las empresas no creo que esto sea un brindis al sol me parece que por una vez porque solemos hablar de precariedad en general

muy concreta muy concreta que no es novedosa estoy de acuerdo para nada es novedosa porque bueno creo que tenemos que ser capaces de aprender

y de si se puede intentar mejorar y en este caso lo novedoso entre comillas que para nada es novedoso pero de lo que difiere de la propuesta española es que

pero que se nos dijo legalmente eso no se puede pedir tal cual bien pues vamos a poner

que estos criterios que vamos a redefinir sean premiados en las contrataciones públicas

yo no comparto que sea al menos exclusivamente un problema de redacción si no yo pido un receso ahora mismo y nos ponemos

el problema no es de redacción el problema es que hay algunos elementos de la iniciativa en la que no estamos de acuerdo y yo no

desacreditado o descalificado como ha dicho usted su propuesta he señalado que no me gusta que no estoy de acuerdo creo que eso

he estado flojito y luego resulta que ustedes me dicen

mayor descalificación podría ser que tampoco lo considero que ustedes digan que lo que

se puede no estar de acuerdo pero no es un brindis al sol es una transacción

y con contenidos concretos y algunos de esos contenidos son los que creo que el partido popular no comparte

también un acuerdo con partido nacionalista vasco y partido socialista de euskadi

el de incorporar ese posible certificado de manera prioritaria como cláusula de igualdad en la contratación pública y el tema de las ayudas y subvenciones creo que esa es la parte fundamental en la que no estamos de acuerdo y no es una cuestión de redacción y yo decía que para nosotros era una cuestión importante fundamental e incluso cuando hemos estado hablando yo he dicho que para nosotros esa era un poco la línea roja porque

diferenciar entre un certificado que efectivamente pueda ser un corte entre las empresas como yo decía anteriormente o que pueda ser simplemente un certificado

está muy bien para su propia promoción etcétera pero no supone una línea de corte efectiva

en el campo de la igualdad y no desprecio los avances pequeños que se puedan dar en absoluto es solo que creo que hoy teníamos una iniciativa que si afinábamos

que un paso pequeño por lo tanto

que la transacción a la que se llega no obvia que en este país la mayoría de las empresas son pymes aquí no estamos hablando de que una empresa de diez trabajadores tenga que poner una guardería

con una iniciativa de este tipo se puede tener perfectamente

a los tipos y diversidades de empresas que tenemos por aclarar así que yo me voy de la tribuna simplemente reiterando que si fuera una cuestión de redacción por nuestra parte no hay ningún problema en hacer un receso y volver a sentarnos pero creo que no lo es

no por aclarar alguna cuestión yo efectivamente señor hernández no creo que sea una cuestión

ustedes planteaban un certificado nosotros un sello que puede ser algo coincidente pero la forma de ponerlo en marcha pues creo que al final no hemos llegado a un acuerdo pero el planteamiento inicial podía ser

es algo que no recogían los grupos que apoyan al gobierno por lo tanto creo que

el grupo proponente como usted como los grupos enmendantes hemos tratado de avanzar con propuestas concretas yo entiendo que el gobierno también pues es más conservador a la hora de plantear

en su iniciativa original de la iniciativa original como en las enmiendas de podemos

nuestra iniciativa es realmente la que es realista porque al final lo que habla es de potenciar un instrumento que ya tenemos que a mí me parece que es importante y ustedes además

de tener que potenciar el portal concilia realmente como una herramienta efectiva de asesoramiento y de acompañamiento a las empresas que quieren

o cómo se puede implantar un plan de igualdad y creo que ese también es un punto esencial es decir está muy bien que planteemos ustedes mediante el certificado y nosotros mediante un sello algo novedoso en las empresas

al certificado de las empresas especialmente familiarmente responsables pero creo que también

que utilizar y potenciar los instrumentos que ya tenemos como es ese portal que actualmente y según a nosotros nos han hecho llegar de distintos colectivos y asociaciones

no se utiliza o no está configurado

instrumento real para las empresas en materia de conciliación por lo tanto quiero aclarar que para nosotros nuestra propuesta era más realista y por eso también entiendo que al ser recogida en parte en la enmienda de transacción pues creo que es un propuesta más realista

sí efectivamente ustedes hablan de igualdad y de conciliación lo han metido en el último momento pero yo creo que el abordaje y yo me he referido en mi primera intervención creo en que si en una sociedad queremos garantizar realmente la igualdad de oportunidades

y son precisamente los dos términos que nosotros hemos introducido a la hora de hablar del sello distintivo euskadi concilia hablamos de igualdad conciliación y sobre todo hablamos de

que no se puede obviar en una comunidad autónoma donde tenemos afortunadamente

que tenemos en la comunidad autónoma vasca y si es más en cada uno de los territorios históricos que es distinto además con especificidades concretas en cada uno de ellos

en cuenta determinados colectivos y colectivos feministas si me parece muy bien

en igualdad como son asociaciones familiares asociaciones de personas con discapacidad

enfermedades mentales con patologías concretas o no tienen problemas de conciliación esas familias que tienen todas estas necesidades por tener unas personas como integrante de un miembro de la familia que tiene unas necesidades específicas en este ámbito por eso yo

porque cuando citamos tenemos el riesgo de dejar fuera a colectivos que tienen mucho que decir y que tienen muchas necesidades en el ámbito de la conciliación

en máximos sino en planteamientos que puedan ser realistas

en relación a estos temas y quiero decir parte han sido numerosas las iniciativas que a nivel estatal se han arbitrado como

medidas en materia de conciliación y de la igualdad

el plan de familia planes específicos nosotros también hemos propuestos un plan de racionalización y conciliación de horarios

la ampliación del permiso de paternidad a partir del uno de enero

ayudas para los autónomos que necesitan reducir su jornada para el cuidado de los hijos regulación del teletrabajo por primera vez en españa

y yo creo que sin duda no son suficientes pero creo que es el camino a

y espero que así sea que el gobierno adopte un compromiso real y efectivo en favor de la conciliación y de la igualdad

pero para nuestro grupo la iniciativa sobre la que vamos a discutir ahora y que traemos a la cámara es una iniciativa importante y sobre un tema importante o al menos para nosotros nos preocupa y nos parece importante porque es una

traemos ahora a debate que pretende aportar

en la lucha contra las conculcaciones y las violaciones de los derechos de las y los trabajadores

que se están dando de manera cotidiana que se están dando

en aumento en el mundo del trabajo y que pensamos

dando la respuesta que necesitan que no es lo mismo que decir que no se haga nada ya lo he dicho en más de una ocasión pero que no están teniendo la respuesta que necesitan y por lo tanto en última instancia se está permitiendo que aumenten las violaciones de los derechos de las y los trabajadores

la precarización de las condiciones de trabajo han ido en aumento en nuestra sociedad creo que eso ya no lo discute nadie hoy en día y es verdad que una parte importante de responsabilidad o de culpa mejor dicho la tiene

en los últimos años las reformas laborales que han permitido esa precarización y que han permitido el aumento del abuso contra los derechos de las

y mentiríamos si dijéramos lo contrario que estos abusos y estas violaciones de derechos ya existían con anterioridad a las últimas

no pretendíamos hablar de legislación laboral ya saben cuál es nuestra opinión sino que pretendíamos traer una iniciativa que pueda reforzar que pueda respaldar la labor que se hace para el control

de que al menos se cumplan los derechos que nos quedan

hoy en día a las y los trabajadores lo cual no es contrario a continuar la lucha por mejorar esos derechos y por una futura legislación laboral desde luego que sea mejor que con la que contamos hoy en día pero la iniciativa que traemos hoy a la cámara es una iniciativa cuyo objeto es

ese proponer una serie de herramientas que si son utilizadas correctamente pueden ser un refuerzo para luchar en última instancia contra la precariedad pero en lo concreto y en lo inmediato para luchar contra los abusos para luchar contra las violaciones de las y los derechos de los trabajadores que como decía es algo que sucede de manera cotidiana con diferentes grados desde las más pequeñas vulneraciones de derechos

graves especialmente en el ámbito de la seguridad en el trabajo con consecuencias muy graves

con consecuencias en muchas ocasiones y además en aumento desgraciadamente también de muertes

en accidentes de trabajo eso es lo que proponemos con esta iniciativa una iniciativa destinada a reforzar

esta lucha y este control en el mundo en el mundo del trabajo porque tenemos fundamentalmente

que tienen en nuestra opinión un papel fundamental en esta lucha por un lado los sindicatos que nosotros creemos que hay que reconocerle el papel importantísimo

a la hora de vigilar y de controlar en las empresas que se cumplan los derechos de los trabajadores y que tienen diferentes vías y herramientas para llevar a cabo esa labor a través de la acción sindical a través de la presión a través de la movilización también a través de la negociación

con osalan con las administraciones públicas en definitiva y

es la inspección de trabajo la inspección de trabajo tiene un papel fundamental y nosotros y para despejar cualquier duda que pueda haber no pretendemos

nada más que reforzar precisamente el papel de la inspección de trabajo nosotros ya lo hemos dicho en más de una ocasión pensamos que en estos momentos inspección de trabajo

una dimensión insuficiente es cierto y nosotros reconocemos como se ha dicho que tiene la mayor plantilla que hemos tenido nunca

la mayor plantilla que hemos tenido nunca seguimos pensando que es una dimensión absolutamente insuficiente y no porque estemos en la oposición y queramos exigir que haya más sino porque alguna vez ya lo he expresado también en esta tribuna si observamos la inspección de trabajo que tenemos

el campo de trabajo al que se tiene que dirigir la inspección de trabajo la diferencia es brutal estamos hablando de una inspección de trabajo con aproximadamente

equivoco en los datos y estamos hablando de una realidad de cientos de miles de

empleadas y empleados y estamos hablando de una realidad de miles de empresas y por lo tanto nosotros

que se debe dimensionar la inspección de trabajo así lo hemos defendido así lo vamos a seguir defendiendo y de hecho conocen ustedes que una de las cuestiones que hemos puesto encima de la mesa para negociar los presupuestos de la comunidad con el actual gobierno

es precisamente esta la de dotar de más medios en este caso humanos

a la inspección de trabajo pero pensábamos también y por eso traemos esta iniciativa que además de

pensamos que hay herramientas para que desde las administraciones públicas colaboremos con inspección de trabajo organizada de una manera efectiva y que por lo tanto pueda hacer el trabajo de la inspección de trabajo más eficaz que

no por falta de profesionalidad de las y los inspectores y subinspectores sino por esa diferencia que hay

y el campo de trabajo al que se tiene que dirigir y las cuestiones que tiene que vigilar y por lo tanto proponíamos

en nuestra proposición no de ley una es la de mejorar y aumentar la coordinación entre las instituciones en este campo

es algo que hemos leído de manera reiterada en diferentes informes del propio gobierno vasco desde los tiempos del señor toña hasta la actualidad y por lo tanto nos parecía importante plantear esta cuestión y nosotros planteábamos que para abordar con eficacia esa colaboración sería importante dotar de los medios necesarios en este caso a los municipios para que puedan colaborar con la inspección

a través de información y otra serie de elementos con los que pueden contar los municipios y que pueden ser valiosos para la inspección de trabajo y proponíamos una segunda cuestión no sé por qué creo que ha resultado hasta algo polémica no acabo de entender por qué

a través de las policías a través de la ertzaintza y determinadas

municipales nosotros pensamos que es un recurso público en este caso el de la policía que podría ser valioso si se utilizase

para colaborar a través de convenios de colaboración efectivos con la inspección de trabajo en euskadi podían jugar un papel importante a la hora de suministrar información a la inspección de trabajo que facilitaría el trabajo de las y los inspectores y subinspectores que tienen cargas de trabajo muy importantes y por lo tanto eso es lo que proponemos

y determinadas policías municipales con la inspección de trabajo y para eso

que en este caso nosotros hablamos de unidades cuenten con la formación necesaria no hace falta ser abogado laboralista pero sí hace falta

a la inspección de trabajo por lo tanto esa es la iniciativa que proponemos

las razones por la que la rechazan pero nosotros pensamos que era una buena iniciativa que puede permitir que

a través de la colaboración con otras herramientas públicas que tenemos y además estamos convencidos de que no solo no es una marcianada porque tenemos precedentes en valencia recientemente un gobierno socialista además ha desarrollado

se tomaron medidas similares y con muy buenos resultados por lo que hemos podido leer por lo tanto básicamente esto es lo que proponemos

refuerce la colaboración entre las instituciones y se dote de medios a los ayuntamientos para que puedan colaborar con la inspección de trabajo y que se utilice la policía la ertzaintza la policía autonómica y también determinadas policías municipales

unidades que puedan ejercer un refuerzo al trabajo que hace inspección de trabajo escucharemos por qué rechazan nuestra iniciativa nosotros pensamos que era una iniciativa que se podía llevar acabo

que desde luego no iba a sustituir la inspección de trabajo que no iba a ir en contra de la defensa de aumentar los recursos y el tamaño de la inspección de trabajo

y para hacer más efectivo su trabajo a través de la colaboración nada más

una iniciativa referente al control de las condiciones de trabajo y cumplimiento

creo que la intención del grupo proponente de elkarrekin podemos de mejorar ese control sobre las condiciones laborales y de seguridad y salud en el trabajo es buena pero

nuestro total desacuerdo con las medidas que proponen en la misma para conseguirlo

derivadas fundamentalmente de la reforma laboral llevada a cabo en el año dos mil doce y reformas posteriores en materias como son referentes a la jornada laboral el control de las horas

o la mayor facilidad para modificar las condiciones de trabajo de los trabajadores por parte de las empresas entre otras también estamos de acuerdo en que se ha de seguir llevando a cabo control sobre el cumplimiento de la normativa por parte de la inspección de trabajo en materia laboral

así como las sancionadoras y no otras personas y además

dentro de la ley veintitrés barra dos mil quince la ley ordenadora de la inspección de trabajo y seguridad social y también

anteriores a la misma elkarrekin podemos propone que se destine a agentes de la policía municipal y del ertzaintza a llevar a cabo labores de inspección de trabajo

creando unidades específicas y ello después de recibir una formación específica en materia de control de condiciones laborales para facilitar luego

y que esta pueda llevar a cabo actuaciones sancionadoras y esto para nosotros es un despropósito por las razones que voy a argumentar a continuación primero

deben de seguir dedicándose a lo que se tienen que dedicar que es al control de los delitos y en dicho control

entre la inspección de trabajo incluso entre la tesorería general de la seguridad social con la policía nacional

y dentro del sistema de inspección de trabajo y seguridad social a través de las actuaciones llevadas a cabo tanto por inspectores de trabajo y seguridad social como por los subinspectores de empleo como por los subinspectores de seguridad y salud laborales es donde se ha de seguir realizando

y realizar los requerimientos y las sanciones que se considere convenientes en aras a conseguir ese cumplimiento y en los casos en los que se considere que se puede haber cometido un delito por parte de una empresa o de un empresario poner en marcha

que existen en este momento y comunicarlo a la fiscalía y a la policía para que ellos lleven a cabo las investigaciones de los mismos eso ya se está haciendo y en segundo lugar le pregunto señor hernández cuánto tiempo considera usted suficiente para que

especializadas dentro de la policía local o la ertzaintza tengan capacidad para saber

y que además tengan que poner la relación con la normativa de empleo y de seguridad social cuánto

tarda un inspector de trabajo en preparar y aprobar unas oposición y dominar todo el temario que se le exige

que al aprobar sea un profesional preparado para ello yo se lo voy a decir señor hernández de tres a cinco años depende del número de plazas que se convoquen año a año es decir

se le exige tanto tiempo como el que hubiera tenido que dedicar en aprobar otra legislatura y usted pretende saltarse todo ello y dar un cursillo

inspección de trabajo policías locales y la ertzaintza pues es imposible que puedan dominar y tener conocimientos suficientes

con un cursillo de formación y la siguiente qué va a ser cuando se produzca un incremento a su juicio le damos a los inspectores de trabajo otro cursillo para que ellos investiguen los delitos pues digo lo mismo rotundamente

cada cuerpo tiene que realizar bien las funciones que tiene encomendadas y no hacer mejunjes que no ayudan y no sirven para nada

formados en los diferentes cuerpos para realizar las funciones que ya tienen encomendadas y luego cuando se necesite actuar coordinadamente se actúa entre los diferentes cuerpos coordinadamente pero también se está realizando esa coordinación en este momento y existen medios para poderlo realizar a través de comunicaciones

o denuncias en la inspección de trabajo no sé a lo mejor próximamente se le ocurren a ustedes que para reducir las listas de espera en osakidetza le demos un curso de formación a los enfermeros o enfermeras

a que le parece un despropósito pues eso es lo mismo el médico ha dedicado mucho tiempo a preparase para ser un buen profesional y no puede suplirse toda esa preparación con un curso de formación a una persona que no ha hecho y no se ha especializado correctamente para realizar esas funciones

como profesional también se asumen responsabilidades de las actuaciones realizadas lo que ustedes proponen

pasa por incrementar las actuaciones desde la inspección de trabajo en el control de la normativa

y aumentar el número de efectivos dedicados a ello por eso desde el principio del año dos mil diecisiete

y a través de la inspección de trabajo con el fin de controlar el fraude laboral y la economía irregular y a nivel nacional en julio

del gobierno socialista de pedro sánchez se ha aprobado por el ministerio de trabajo migraciones

el plan director de la inspección de trabajo para un trabajo digno dos mil dieciocho dos mil veinte aprobado el veintisiete de julio del dos mil dieciocho

con cincuenta y nueve medidas operativas y veinte organizativas y dentro de las cuales se combinan medidas inmediatas y medidas a largo plazo siendo las primeras dos planes de choque

un plan de lucha contra el fraude en la contratación temporal y otro contra los abusos en la contratación a tiempo parcial reformar también la lucha contra la economía irregular y afrontar nuevas modalidades dentro de la economía colaborativa dentro de plataformas

de los jóvenes y en la lucha contra la siniestralidad laboral la inspección de trabajo del país vasco participa en la ejecución de los dos planes ya que el plan director afecta a todos el sistema de la inspección de trabajo y seguridad social y sus objetivos

de trabajo y justicia y en los que la inspección de trabajo de euskadi lleva trabajando intensamente desde principios del año dos mil diecisiete como ya he indicado

conjunta extraordinaria realizada por la inspección de trabajo del estado y la inspección transferida al gobierno vasco en euskadi se han regularizado hasta septiembre

lo que supone la cuarta parte de los convertidos en indefinidos es decir uno de cada cuatro contratos convertidos en indefinidos lo fueron por haberse exigido así por parte de la inspección de trabajo se trata de contratos temporales y parciales en fraude de ley que pasan a ser

en indefinidos según datos facilitados por el departamento de trabajo y justicia hasta junio la cifra de los contratos regularizados ascendía a cuatro mil trescientos treinta y cuatro contratos es decir

en el último trimestre se han transformado a través de esa campaña extraordinaria mil trescientos veinte contratos más y esto en esta primera fase se han

que se lanzaron en agosto del dos mil dieciocho a diferentes empresas y que han tenido un importante efecto disuasorio para que las empresas regularicen su situación

que no debían serlo fruto

con contratos a tiempo parcial pero realizando jornadas completas de manera abusiva por sus empleadores

contratos temporales fraudulentos el cincuenta y siete coma ocho por ciento de los contratos detectados y se va a iniciar la segunda fase de esa campaña con la visita inspección de forma presencial a las empresas que no han regularizado la situación de sus trabajadores temporales y parciales y que se inicia en este mes de octubre

también se van a llevar a cabo una oferta pública de empleo en octubre para reclutar trescientos cincuenta y tres nuevos inspectores y subinspectores con el objetivo de sumar

a dos mil veinte amaitzen joan y va a suponer un incremento del veinticinco por ciento de la plantilla es por ello

a apoyar y a votar a favor de la enmienda a la totalidad conjunta presentada por el partido nacionalista vasco y el partido socialista porque es la que va en la línea en la correcta línea que le he indicado yo el seguir realizando esas intensas campañas de revisión de los contratos

el número de efectivos dentro de la plantilla de inspección de trabajo

sea apoyada por otros grupos de la cámara este es el camino que hay que seguir y no otro que no sirve para nada y sobre todo es contrario

le diré que para nosotros es esencial que la administración laboral despliegue todo su potencial potencial facilitador de la correcta aplicación de las condiciones de trabajo mediante el ejercicio de las funciones inspectoras y consultoras y mostrando las precisas fórmulas del correcto cumplimiento y desarrollo de la normativa laboral

de los planteamientos básicos de su iniciativa le diría que tenemos claras coincidencias sin ninguna duda detectamos esa preocupación en la ciudadanía es una preocupación compartida compartimos percepción comparto percepción con usted señor hernández

con dos dimensiones cuantitativa y cualitativa en forma de objetivo incrementar el empleo es decir reducir el desempleo y por otro lado mejorar su calidad

está más centrada en este segundo objetivo compartimos comparto también con usted

todo su potencial como decía yo antes para mejorar estas situaciones compartimos la necesidad de impulso institucional la necesidad como usted dice en su justificación de plantear iniciativas que lleven a conseguir la mejora sustancial de las condiciones de trabajo hasta aquí sintonía nosotros lo tenemos claro y en ese sentido me gustaría hacer referencia a nuestro programa electoral

más del treinta por ciento corresponden a esta preocupación general de ellos seis concretos compromisos en el ámbito del debate de hoy seis compromisos en esta concreta área estratégica que se despliegan en once iniciativas y cuarenta y ocho concretas actuaciones y estos compromisos estas iniciativas y estas actuaciones quedaron plasmaron entre el acuerdo del partido nacionalista vasco y el partido socialista en el acuerdo que firmaron el veintidós de noviembre de dos mil dieciséis y ese acuerdo se materializa en el ámbito

y en su programa de gobierno en un firme compromiso por trabajar conjuntamente con los agentes sociales para mejorar las condiciones de trabajo en este sentido el gobierno entiende que la inspección de trabajo es una herramienta fundamental para la garantía de la calidad y el cumplimiento de la legislación laboral

sin duda comprometido con el reforzamiento de los servicios de inspección un compromiso con el desarrollo de medidas concretas acciones de información acciones de vigilancia acciones de inspección destinadas a detectar posibles irregularidades

y yo y es en este momento en el momento de las concreciones donde esa sintonía se desvanece pero antes de centrarme en la concreción de las propuestas y su materialización en una determinada acción

creerse el diagnóstico y creer en la solución a aplicar creerse las medidas que se plantean tener determinación en esa creencia análisis deber compromiso propuesta concreta y acción de lo que hablábamos

yo me creo nuestra concreta propuesta yo creo que la acción que defiendo ayuda de forma importante a conseguir la solución le pregunto señor hernández usted cree en su propuesta usted cree en su propuesta usted cree que en

cree en lo que nos plantea en esta iniciativa nos dice usted y le voy a citar

de trabajo podría ir en la línea de una de estas líneas de trabajo podría ir en la línea de podría ir

su propuesta de solución es podríamos ir probando

y esto en el ámbito del empleo me lo pone muy difícil ya solamente con la actitud

y yo yo nunca definiría su iniciativa como usted ha dicho como una

pero me lo pone muy difícil para no calificarla de idea inesperada sin sopesar es decir ocurrencia

y es que cuanto más profundizó en ella en el detalle de la parte propositiva mayor dificultad tengo para retirarle esa calificación cuál es la acción concreta que nos plantea no ese maquillaje del que hablaba dimensionar la inspección en su introducción

poner a los ayuntamientos y le cito a controlar las condiciones laborales en las empresas radicadas en ellos uno dos desarrollar y le cito unidades específicas de inspección de trabajo en la ertzaintza y en las policías locales eso es lo que nos plantea

eso propone nosotros hemos enmendado a la totalidad esta proposición no de ley

ordenadora del sistema de inspección de trabajo en su artículo dos recoge los principios ordenadores del sistema de inspección

la función inspectora en el orden social a los funcionarios de la inspección

es la única competente respecto a los contenidos de la función inspectora pero la razón jurídica no es la más importante para mí más allá de la razón de esta razón legal más allá de venir recogida la ley mi argumentación tiene una razón conceptual

son herramientas al servicio de la sociedad y la administración pública tiene la obligación de optimizar la utilización de esas herramientas para dar respuestas a las necesidades para dar respuestas a los problemas con los que se enfrenta una sociedad siempre entendido que

es un conjunto de herramientas una caja de herramientas y un estado de derecho avanzado tiene que progresar sistemáticamente en la utilización de herramientas cada vez más adecuadas más adaptadas al objeto que se persigue creo firmemente

cada vez más precisas posibilitando la especialización

y traigo a colación el símil del derecho como una caja de herramientas porque se ha utilizado más veces en esta cámara no hace mucho tiempo recuerdo el señor arzuaga refiriéndose a algunas medidas del anterior gobierno del estado

únicamente de una herramienta de toda la caja de los martillos

esto es complejas y avanzadas desde la racionalidad y proporcionalidad en su utilización la competencia no se debe dispersar creo que no es consciente del impacto real que su propuesta produciría nos proponen incrementar funciones de órganos

en lugar de potenciar desde la racionalidad la colaboración entre servidores públicos yo me pregunto también si es conocedor de la realidad de las policías locales en euskadi

donde los recursos existentes agotan sus posibilidades en el cumplimiento de las competencias que le son propias

además de todo lo anterior me preocupa mucho que pase por alto los resultados tan positivos de los que incluso la prensa se hace eco resultados que son consecuencia del empleo sistemático por parte de este gobierno de la sofisticadas herramientas a las que acabo de referirme

revisión de los contratos laborales que le recordaba con un montón de datos la señora sánchez hace un momento

su propuesta en dos puntos hemos enmendado a la totalidad proponiendo por un lado que a través de la inspección de trabajo y seguridad social única competente

el gobierno el gobierno vasco continúe desarrollando esas intensas campañas continúe utilizando esas precisas herramientas

a fin de que estos se mantengan como eso como herramienta fundamental para la garantía de la calidad y el cumplimiento de la legislación laboral

plantéenos la utilización de herramientas más precisas y le invito en este momento a votar nuestra enmienda

gracias señora presidenta buenas tardes ya a todos

la verdad es que muchas de las cuestiones que yo voy a exponer aquí ya se han expuesto

por otros representantes y evidentemente no solamente en el día de hoy sino que también en otras ocasiones porque como también se ha dicho aquí

el tema del cumplimiento de las condiciones laborales el tema del empleo de la calidad en el empleo de evitar la precariedad laboral en definitiva de evitar también la siniestralidad laboral

debatido en muchas ocasiones en esta cámara hace un año debatíamos una moción de eh bildu referida a las medidas a adoptar por ejemplo para los accidentes de trabajo a principios de

esa misma cuestión con relación a la necesidad de reforzar la inspección de trabajo y lo hacíamos también en comisión cuando han comparecido

han hablado de precariedad laboral que nos han hablado de las causas y de las medidas a adoptar para prevenir y evitar la siniestralidad laboral

vigilar el cumplimiento de las condiciones laborales

yo estoy de acuerdo que la responsabilidad por el cumplimiento de las condiciones laborales por el cumplimiento de la calidad

de la prevención de riesgos laborales es compromiso de todos y es una tarea de todos de los empresarios de la ciudadanía de los sindicatos de la administración y estoy de acuerdo con lo que se establece en la iniciativa que se ha expuesto yo creo que aquí por parte de todos los grupos que esa preocupación por el empleo

por la siniestralidad laboral es una preocupación común es una preocupación de todos los grupos de esta cámara es verdad señor hernández que tengo que decirle que en esta ocasión usted ha sido un poco menos catastrofista de lo que ha sido en otras ocasiones que a veces ha parecido que no se hacía nada que en euskadi la inspección de trabajo que osalan estaba

yo creo que todos también pudiéramos estar pero también es cierto y hay que reconocerlo que se están adoptando medidas precisamente para hacer más de lo que se hace porque yo estoy de acuerdo con usted que hay ámbito de mejora claro que lo hay siempre que haya un incumplimiento de una condición laboral siempre que siga existiendo la precariedad en el empleo siempre que haya un solo accidente laboral

ámbito de mejora no le quepa ninguna duda pero como digo es cierto que la inspección de trabajo la inspección de seguridad social que osalan está actuando y la última vez por ejemplo

por lo tanto yo creo que estoy de acuerdo con usted como lo estamos el resto de los grupos en que es necesario vigilar el cumplimiento estricto de la normativa laboral es necesario impulsar

que se exijan medidas de seguridad que se exijan medidas de prevención que eviten la siniestralidad laboral y los riesgos psicosociales y denunciar cuando estos no se cumplan y por lo tanto creo que

es tarea de todos y por lo tanto creemos que las inspecciones deben de reforzarse y yo creo que en muchas ocasiones hemos llegado a acuerdos aquí la última vez no la anterior firmamos una enmienda en ese sentido

se va a incrementar sus medios personales como ha dicho la señora sánchez pero estando de acuerdo con el objetivo de la iniciativa sin embargo que discrepar también sobre los medios que se proponen porque que sea una cuestión de todos no quiere decir que todos tengan que hacer de todo nosotros claro que creemos que es necesario reforzar la plantilla y los medios personales y materiales de la inspección de trabajo pero

los que tienen que velar por el cumplimiento de las condiciones laborales porque son ellos

ni la policía local ni los ayuntamientos y no lo son

primero se lo ha dicho la señora sánchez la inspección laboral requiere una especialización que no es tarea ni rápida ni sencilla abarca conocer la totalidad de la extensa y compleja normativa y ello requiere su tiempo si usted por ejemplo va a la memoria de la fiscalía

contra los derechos de los trabajadores se hace precisamente referencia a la complejidad y existe una especialización entre los fiscales

de los procedimientos y muchas de las causas se les solicita que se haga una declaración de complejidad precisamente por el tiempo y el conocimiento que implica pero además de la complejidad una complejidad

mucho tiempo y mucho esfuerzo creo que también es necesario distinguir

que es el delito una cosa es la persecución de la precariedad laboral de la siniestralidad laboral del cumplimiento de las condiciones de trabajo de las horas extras

y otro es la vulneración de los derechos de los trabajadores que están tipificados como delito en nuestro código penal lo primero es competencia de la inspección laboral lo otro requiere la intervención de la ertzaintza en su caso como policía judicial al auxilio de los tribunales

la ertzaintza como le digo como policía judicial tendrá que intervenir cuando

trescientos once a trescientos dieciocho delitos contra los derechos de los trabajadores cuando esas conductas delictivas se produzcan evidentemente ahí tiene que estar la ertzaintza auxiliando en su caso a los tribunales como policía judicial pero desde luego no vemos

ni la policía local se encarguen de controlar el cumplimiento de las condiciones laborales

las declaraciones del impuesto de sociedades nosotros no creemos que para eso están los inspectores de hacienda

y se viera que hay conductas delictivas por ejemplo que ha habido la comisión de un delito fiscal entonces sí entonces tendría que intervenir la policía tendría que intervenir

auxiliando a los tribunales judiciales una cuestión

de los inspectores de medio ambiente y otra muy distinta por ejemplo de unidades como la udef

como la actuación para la persecución de los delitos contra los derechos de los trabajadores

la ley veintitrés barra dos mil quince ordenadora del sistema de inspección de trabajo y seguridad social es la que establece que esa competencia la competencia de la inspección corresponde a los inspectores de trabajo

es más en respuesta a una pregunta suya y por eso no le leo

una pregunta suya se le informó de las actuaciones del dos mil diecisiete y de las actuaciones yo aquí tengo las del primer semestre aunque luego allí tengo un resumen de las del primer semestre del dos mil dieciocho en el que se dicen todas las actuaciones

en ámbitos como las relaciones laborales la prevención de riesgos laborales y el empleo

lo ha puesto de manifiesto cuáles son las actuaciones que se iban a hacer como es el plan director

de choque que están en marcha por lo tanto como ve los inspectores en lo que es su ámbito de actuación

más inspecciones y más profusas podemos estar de acuerdo con usted y en ese sentido por eso nosotros no enmendamos su iniciativa porque cómo se puede conseguir más

y más profusas y más actuaciones pues pasa por reforzar la inspección de trabajo que lo hemos pedido en otras ocasiones y que el gobierno está atendiendo a esa petición y se está haciendo por eso

que es un mayor cumplimiento de las condiciones laborales en euskadi

se consigue a través de una serie de medidas que ya se han solicitado por varias veces en esta cámara y que hoy aquí

a votar de manera favorable pero que sí que se están atendiendo yo creo por parte del gobierno y con relación

vamos a votar en contra porque la primera de las cuestiones hace referencia a lo que yo decía a esa petición y la segunda porque ya es un clásico de eh bildu está el dicho de dónde vas manzanas traigo pues con eh bildu es donde

da igual la iniciativa que se trate que es no no no nosotros queremos la competencia en euskadi y aquí todo pasa porque la competencia esté

momento y ocasión es bueno para reclamar la competencia y el ámbito propio de relaciones laborales que ya es un clásico en este tipo de iniciativas

aunque yo creo que intuyo que no es que sí tuviéramos la competencia la inspección de las condiciones laborales

entraría la ertzaintza y la policía local o no yo creo que no pero eso lo tendrá que

claro que creo en la iniciativa que traigo a la cámara señor aiartza si no no la traería créame

claro que creo tal vez y yo pueda reconocer que a mí se me puedan escapar algunos detalles técnicos de cómo luego se llevan las cosas a la práctica

iniciativa y además creo que ni es un despropósito como decía la señora sánchez ni es una ocurrencia como decía en el sentido de idea inesperada entre otras cosas porque la idea ni siquiera es nuestra y ya he explicado antes que

algunas prácticamente idénticas ya se han llevado a la práctica en otros lugares y que hay sindicatos algunos sindicatos que han propuesto este tipo de medidas porque nosotros

en mi intervención anterior lo que proponemos cuando hablo

estaba haciendo la introducción porque hemos venido defendiendo que

está efectivamente en esa parte en la que parece que sí coincidimos pero que es absolutamente insuficiente como está hoy en día que tenemos una inspección de trabajo que es absolutamente insuficiente para las tareas que tiene que abordar y para el mercado de trabajo en el que trabajamos las y los trabajadores

la vulneración de los derechos de las y los trabajadores

en cuáles de ellos son ilícitos penales o cuáles son ilícitos administrativos son violaciones de los derechos de las y los trabajadores

haga el papel de los inspectores de trabajo no es eso lo que estamos proponiendo no no es eso lo que estamos proponiendo en esa iniciativa por lo tanto no puedo contestar a la señora sánchez no sé exactamente yo no voy a determinar cuánto tiempo de formación necesitarían

lo que sí tengo claro es que no necesitan la misma formación que un inspector de trabajo porque no estamos proponiendo que hagan el trabajo de las y los inspectores de trabajo no es eso estamos proponiendo unidades que vayan a colaborar con inspección de trabajo pero unidades que tengan un mínimo de formación

fundamentalmente en mi opinión serian de información y una cosa que creo que es muy importante también de disuasión porque

de las violaciones de los derechos de las y los trabajadores que se cometen en el día a día igual no son ilícitos penales como se ha dicho hoy

pero son pequeñas violaciones que se cometen todos los días

y que es muy complicado para la inspección de trabajo llegar a la realidad concreta de cada una de ellas yo no he sido menos catastrofista que en otras ocasiones porque en otras ocasiones creo creo igual me equivoco y tengo mala memoria que también puede ser creo que siempre he reconocido que algo se hace yo nunca he dicho aquí que no se haga nada en esta materia lo que siempre he puesto de manifiesto es que con lo que tenemos con la inspección de trabajo que tenemos

la problemática la realidad dura de la vulneración de derechos de las y los trabajadores que sufrimos día a día en nuestro país y que van

pero sí soy igual de catastrofista en describir esa realidad porque la realidad esa realidad en muchísimos puestos de trabajo es una realidad jodida es una realidad jodida y yo conozco muy bien el trabajo que hace gente como la señora sánchez que si no recuerdo mal es inspectora de trabajo

pero sé también hasta dónde pueden llegar y conozco muy bien la desesperación de muchísimas y muchísimos trabajadores cuando ellos saben lo que están sufriendo y ven la dificultad para que realmente se tomen medidas y por eso creo que esta iniciativa es una buena iniciativa que podría ayudar a inspección de trabajo

desde luego seguramente yo ahí no sería la persona más indicada para desarrollarla pero esto se puede hacer y además está previsto en la ley

portavoces de los grupos me han hablado de la ley y la ley prevé precisamente la colaboración con las fuerzas de seguridad y por lo tanto

que se organice esto que se haga esto eso es lo que estamos diciendo insisto no estamos proponiendo para que no quede duda no estamos proponiendo

a las y los inspectores de trabajo estamos proponiendo que se refuerce

desde las herramientas que tenemos en la administración pública y si hay que afinar

no nos ha llegado ninguna contra propuesta más allá que la transacción que nos dice que el gobierno siga haciendo lo que está haciendo y además en este caso me parece que excesivamente autocomplaciente

cosa que yo no puedo compartir eskerrik asko hernández jauna

a ver señor hernández una cosa es colaborar que yo he hablado también de la necesidad de colaboración entre cuerpos y entre administraciones y otra cosa es hacer las funciones y le voy hablar de una tercera razón

le he hablado de dos razones pues le voy a dar una tercera y le voy hablar de la presunción de certeza usted dice no se les da formación para que luego le transfieran información y eso lo puedan utilizar para poder llevar a cabo actuaciones sancionadoras

que no te de presunción de certeza de lo que tú has visto no le sirve al inspector de trabajo

para poder llevar a cabo esa actuación sancionadora porque no cuenta con presunción de certeza porque la normativa no se la reconoce

pero para eso exactamente se hace ahora mismo una denuncia una comunicación entre administraciones cuando se detectan algo entre unos u otros es que eso se hace

y le he dicho más también desde la tesorería general de la seguridad social cuando ve que hay algo constitutivo de delito para que desde el sitio donde se tiene que investigar los delitos que desde fiscalía o desde las diferentes policías se realice es que eso

porque para eso ya están los mecanismos que existen que es la comunicación a través de esa colaboración vía denuncia o vía comunicación para que se efectúe la actuación de la inspección de trabajo y no se necesita nada más

no va a tener ningún efecto lo que haya podido ver porque no cuenta con la presunción de certeza pasó lo mismo hace tiempo con los técnicos de osalan

hace años los técnicos de osalan no contaban con la presunción de certeza de tal forma que lo que veía un técnico de osalan no podía ser utilizado por un inspector de trabajo para efectuar su actuación sancionadora y los técnicos de osalan

en materia de seguridad y salud laboral pero sin embargo como no contaban con esa presunción de certeza no se podía utilizar lo que ellos hubieran podido ver y a lo mejor iba el inspector de trabajo y ya no existían las condiciones que había exactamente iguales a las que vio el técnico de

pasa con lo que usted ha propuesto o sea vale la denuncia vale la comunicación que eso realizar entre cuerpos y entre administraciones con lo que hay y cada uno que se dedique a realizar el trabajo para el cual está formado los policías a perseguir delitos y la inspección de trabajo a efectuar las actuaciones en vía administrativa que tiene que efectuar y realizar la colaboración que sea necesaria

llanos de la diferencia entre el lícito administrativo y el lícito penal no me voy a extender ahí más es que hay unas diferencias cada uno tiene que hacer su cometido

con el mayor número de efectivos posibles para tener el mayor número de actuaciones que es lo que he dicho que se está haciendo y se está haciendo bien porque aquí en el país vasco hemos sido pioneros yo ya he dicho que desde el departamento de trabajo y justicia desde el principio del dos mil diecisiete ya vimos la necesidad de tener que efectuar esas campañas para controlar los contratos temporales y los contratos a tiempo parcial ahora a nivel nacional

han puesto en marcha en julio el gobierno de pedro sánchez el plan director que acabo de decir de la inspección de trabajo dos mil dieciocho dos mil veinte donde ser van a incrementar

y que se han iniciado y esas campañas extraordinarias en dos fases que se han iniciado desde agosto y desde este verano y que van a continuar con las visitas presenciales ahora

ahora a partir de octubre y además se van a incrementar en un veinticinco por ciento la plantilla de inspectores de trabajo a nivel nacional cosa que no ha ocurrido

o sea que estamos por la línea correcta nosotros vemos esa necesidad pero lo hacemos por la vía que vale por la vía correcta por la que da

quitar efectivos de policía de lo que verdaderamente tienen que realizar

donde no tienen no cuentan en muchos ayuntamientos como bien ha dicho la señora otamendi con personas o con personal para poder realizar esas funciones cargarle con más funciones que además no le corresponden y que no van a servir además como he dicho absolutamente para nada que si ven algo

como lo ha venido haciendo no hace falta cambiar en ese sentido absolutamente nada por eso no estamos de acuerdo

y la señora llanos ha dicho que iba a votar en contra de la iniciativa planteada por elkarrekin podemos yo lo que espero es que vote a favor de la enmienda a la totalidad

que hemos presentado el grupo nacionalista vasco y el grupo socialista vasco porque es la que va

eskerrik asko mahaiburu andrea en primer lugar sí quería hacer un comentario

y la materialización de su enmienda fundamentalmente del punto dos de su enmienda únicamente comentarle que además de compartir

políticas sociolaborales y de empleo contenidas en la base quinta no procede como respuesta hoy a la propuesta que somete a debate el señor hernández hoy señor hernández

inicialmente de posible marcianada yo nunca lo

a demostrarnos que no era yo creo que hay

en demostrarle que y por eso yo he utilizado el concepto ocurrencia que es idea inesperada sin sopesar

que inicialmente a todos nos preocupa sin ninguna duda a todos nos preocupa y compartimos lo que usted está queriendo trasladar en esa iniciativa

de la aplicación de la acción concreta que usted pretende creemos o entendemos y es lo que nosotros le trasladamos que puede ser mucho más graves de lo que aparentemente usted ha sopesado

la señora otamendi le hablaba de la realidad de los pequeños ayuntamientos las diferencias entre ilícitos administrativos e ilícitos

y muchísimas otras cuestiones yo le hablaba de la especialización de las herramientas y yo creo que de lo que estamos hablando es de afinar el enfoque

solución estructural o solución coyuntural la estructura está la actual estructura está

más la actual estructura de la inspección y la competencia es de la inspección para estas cuestiones puede estar o se puede necesitar

esa realidad esa estructura bien de acuerdo hablemos de eso

pero está ahí está esa estructura y está esa competencia competencia exclusiva de los funcionarios de la inspección

y la colaboración también está está y se lo han explicado y eso es una solución coyuntural un juez necesita que funcione de una determinada manera y solicita una solución y es coyuntural pero usted no propone eso en su iniciativa usted no propone eso en su iniciativa y es lo que yo le he querido trasladar

porque usted lo que dice usted lo que dice y la leo es crear unidades específicas de inspección

crear sí sí léalo crear unidades específicas de inspección

eso es lo que nos plantea y eso es un cambio de la estructura realmente yo creo y le vuelvo a decir que es importante que planteemos la utilización de herramientas cada vez más precisas eskerrik asko

llanos andrea bertatik sí señora presidenta con su permiso desde el escaño solo por matizar dos pequeñas cuestiones

ahora ha dicho otra cosa pero es que en su iniciativa habla de verificar el cumplimiento de la legalidad de la policía en la justificación y que apostamos por aprovechar estos recursos para hacer frente a la lacra social es decir para que se encarguen de vigilar en el punto uno

y crear unidades específicas de inspecciones de trabajo para que traspasen información es decir para que inspeccionen en definitiva y pasen esos datos a la inspección de trabajo

a la que yo no le resto ni un ápice de buena voluntad pero

de inspectores de trabajo y decía en su réplica que es que a veces a los inspectores de trabajo les es complicado llegar

no será mejor articular medidas para que esa dificultad se venza por parte de los inspectores de trabajo que son los encargados de llevar a cabo

a petición de la inspección de trabajo o suministrándole ella a su vez datos a la inspección de trabajo

toda la cámara es que también para el partido nacionalista vasco las competencias siempre están mejor aquí nada más gracias

ezeko egoerak aurkitzen dituztela en el ámbito de la educación y especialmente en la etapa adolescente persiste una elección diferenciada de proyecto educativo y profesional por motivos de género así las profesiones vinculadas a la educación salud cuidados o trabajo social están fuertemente feminizadas y sin embargo las vinculadas a la informática industria o tecnologías fuertemente masculinizadas en las redes sociales las niñas y adolescentes están más expuestas al ciberacoso sexista y también existe lo que se conoce como segunda y

la trata con fines de explotación sexual la mutilación genital femenina y los abusos sexuales son las manifestaciones más graves de las desigualdades y violencia que tienen que afrontar las niñas y adolescentes por el mero

estos son algunos ejemplos de fenómenos y vulneraciones de los derechos que se están produciendo en el mundo y en euskadi y que tenemos la voluntad de prevenir revertir y erradicar por todo ello bat el parlamento vasco declara que las niñas y las adolescentes en euskadi y el mundo por el mero hecho de ser mujeres

que sean necesarias para mejorar la situación de las niñas y adolescentes poniendo en el centro de todas las políticas públicas el principio del interés superior de la niña hiru el parlamento vasco se compromete a continuar trabajando para avanzar hacia la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres y la erradicación de las violencias machistas ya que son las principales causas de las situaciones de vulneración de derechos que tienen que afrontar las niñas y adolescentes por el mero hecho de ser mujeres